helduko dituena un presupuesto expansivo e inversor con un ambicioso plan para la transformación económica de euskadi

como usted decía para acelerar esta fase de recuperación con una clave

porque será la inversión efectivamente la inversión pública la que impulse las grandes apuestas para los próximos años y nos permita abordar

la energético climática y la social y sanitaria el año dos mil veintidós será un presupuesto expansivo e inversor

la ventana de oportunidades sin precedentes que existe hasta el año dos mil veintitrés

la covid diecinueve ha causado una recesión económica a nivel mundial de una intensidad desconocida en los últimos tiempos hay que remontarse a la segunda guerra mundial

en euskadi el impacto económico se ha traducido en la caída del pib del año dos mil veinte del nueve coma cinco por ciento algo sin precedentes como les decía en las últimas décadas la caída de actividad ha afectado de modo general a todos los sectores y de modo particularmente intenso a la hostelería comercio minorista y actividades artísticas y creativas

servicios desde el primer momento la respuesta de la política económica ha sido contundente para aliviar los efectos económicos en el corto plazo y evitar que se conviertan

la comisión europea ha decidido impulsar una política fiscal expansiva permitiendo una desviación temporal de los requisitos a cumplir en estabilidad presupuestaria

hasta el año dos mil veintitrés y ha puesto además en marcha una medida excepcional

debido a la estrategia financiera que hemos llevado a cabo los años previos a la pandemia y además el treinta de septiembre de dos mil veinte cerremos en la comisión mixta de concierto económico unos acuerdos bilaterales con el estado que nos permiten emplear todos nuestros recursos

necesitamos para salir de esta crisis cuanto antes y que sin duda pasa por el impulso inequívoco de la inversión fíjese para ser consciente del esfuerzo presupuestario realizado basta señalar que habíamos presentado un presupuesto equilibrado para dos mil veinte y el descenso de la recaudación de los tributos concertados

nos ha conducido a un déficit del uno coma uno por ciento del pib voy a ir concluyendo

apurando los límites permitidos vamos a ampliar toda la munición disponible para ambicionar un plan de inversiones que actúe como palanca para incrementar el pib potencial de la economía vasca sería poco coherente

y no aprovechar al máximo su relajación les invito en este sentido a todos los partidos de esta cámara a ser partícipes

y apoyar al gobierno en un momento crucial que va a marcar sin duda el futuro de la sociedad vasca eskerrik asko eskerrik asko azpiazu jauna gai zerrendako bigarren puntua

aurrekontuen jarraibideei buruz he oído con atención lo que nos ha dicho y resumiéndolo casi a un titular diría que

derivada de la covid diecinueve y sus consecuencias económicas y sociales

de la acción de gobierno eta aipatu dituzu besteak beste herrialde erronka ventana de oportunidad

eta nik ez dut hori ikusten hain zuzen ere egiten ari zareten moduan mire le voy a leer un texto que he leído en estos tiempos de pandemia del

de nuestro entorno que dice que los responsables políticos siguen siendo lentos a la hora de aceptar las responsabilidades de sus decisiones pero esos mismos responsables políticos

por las dudas por ejemplo sobre las vacunas o por no seguir los consejos oficiales incluso cuando esos consejos llegan

pero no es esto exactamente en lo que quería subrayar porque añade la participación del público en la toma de decisiones genera confianza y es posiblemente más importante en una emergencia cuando las libertades civiles se ponen en riesgo y la culpabilización hace perder la confianza del público esta reflexión

quiere decir contar con sus principales actores a todos los niveles no puede ser que la ciudadanía nos moleste y que la reclamemos únicamente

porque la universidad la comunidad científica las asociaciones los sindicatos

talento probablemente mayor del que se recoge entre las paredes de este parlamento horregatik uste dut agenda berri bat beharrezkoa dela

esta cámara ha aprobado el dictamen de la nueva ley antipandemia este dictamen se basa en un balance de lo acontecido y realizado plantea medidas de cara a los objetivos estratégicos de futuro y mejora el modelo de gobernanza ustedes no han querido participar en este ejercicio colectivo

avanzamos paso a paso mientras ustedes se enrocan en la oposición junto al partido popular ciudadanos y vox en todo caso seguimos considerando sus propuestas pero les pido un mínimo de realismo

señora vicelehendakari los socialistas nos presentamos a las pasadas elecciones

con un planteamiento claro y con un compendio de propuestas sectoriales que pretendían definir los objetivos que tenemos como sociedad vasca en la próxima década y el camino

pero junto con esto que es lo importante nos tocó atender lo urgente es decir plantear medidas de choque para atender a la ciudadanía vasca y su economía ante una de las situaciones de emergencia más graves a las que hemos hecho frente en décadas y para esto nos fijamos

no dejar a nadie atrás relanzar la economía y el empleo sabíamos por experiencia que hay muchas formas de salir de una crisis

menos cohesionada o con menos falta de oportunidades y un estado de bienestar devaluado

vascos asumimos el reto y todos los indicadores indican que acertamos al asumirlo los socialistas y usted misma señora vicelehendakari asumiendo de primera mano la cartera de trabajo y empleo nos hemos volcado en este gobierno en la recuperación social y económica de euskadi lo urgente pero sin renunciar a la mirada larga que nos permitirá afrontar los grandes

huyendo de cualquier tipo de triunfalismo lo cierto es que hoy los datos socioeconómicos apuntan a una recuperación progresiva de la economía y el empleo

a la seguridad social que hemos conocido este mes suponen que en términos de paro registrado se ha recuperado más de un ochenta por ciento del empleo destruido durante la pandemia y el setenta por ciento en términos de cotizantes pero también huyendo de cualquier tipo de catastrofismo lo cierto

estructurales dentro del mercado de trabajo como la excesiva temporalidad la parcialidad no deseada la cronificación del desempleo o las desigualdades que persisten en el ámbito de las mujeres por todo ello y ante los datos globales que apuntan en el sentido de la reconstrucción social y económica de euskadi nos parece importante preguntarle

el departamento de trabajo y empleo para preparar este momento de salida de la crisis gracias eskerrik asko rico jauna erantzuteko mendia andrea zurea da hitza

y aquí en euskadi hemos visto sobre todo la gran capacidad de resistencia de nuestro tejido productivo y nuestra capacidad de recuperación nunca este departamento ni este gobierno ha dado señales triunfalistas porque no sería responsable

en paro que antes de que empezara a la pandemia pero son veintitrés mil menos que cuando empezó la crisis

han recuperado ya su actividad hemos sabido entre todos proteger el empleo pero nuestro departamento nos volcamos en preparar no el cuánto ni el cuándo sino el cómo salir

de salir juntos de salir con más calidad en el empleo con más protección de quienes no lo encuentran y de quienes no están en disposición de acceder a él

que es lanbide en enero comenzamos su proceso de transformación profunda para darle la vuelta y en febrero pusimos sobre la mesa de los agentes sociales una estrategia de empleo que eleva la mirada para definir la euskadi en la que vamos a vivir con calidad inclusión e igualdad cuenta con aportaciones de los empresarios y de los sindicatos la aprobamos en el consejo de gobierno y en mayo ha recibido las aportaciones de todos los grupos de esta cámara y a la vez comenzamos la elaboración articulada de una nueva ley

la abriremos al debate de esta cámara un borrador que busca sobre todo atender nuevas realidades

pensionistas y hogares con menores y ser mucho más accesible para quienes la necesiten y más exigente con quienes pretendan engañar todo este proceso

con nuestro sistema vasco de garantía de ingresos si lanbide no está preparada para atenderlo no podemos hablar de inclusión real si no garantizamos un empleo de calidad o si no activamos el derecho a la formación y la activación laboral a lo largo de la vida

y hemos puesto ya en marcha todos sus elementos transformadores en este momento a la vez que velamos por la salud y la protección de los derechos de las personas trabajadoras tenemos

y el palo que lo sostiene es el mismo el diálogo social todo lo que hace este departamento tiene esa vocación de concertación y acuerdo y eso es lo que hará posible la reconstrucción social y económica de euskadi que necesita de la reconstrucción de los consensos sociales y políticos en euskadi porque de eso depende nuestro presente

y la pandemia la verdad es que nos ha pasado factura zenbat hauetako zenbat sartu gara

tdp anorexia de eso todavía hablamos menos el suicidio no existe el duelo lo apartamos

de la psiquiatría infantil de las urgencias en psiquiatría infantil de cómo

les está repercutiendo en la salud mental gaur

hitz egiteko momentua badela por ello le pregunto qué plan tiene para reforzar

es qué valoración hago de la situación sanitaria en euskadi beraz osasun egoerari buruz egiten dudan balorazioa

en salud mental eso sería un primer paso porque más adelante

fuera de la ley de salud pública que nos toca tramitar en breve todo lo que tiene que ver con la salud mental no puede ser subsidiaria esta cuestión el propio instituto

y también de que aumentan las visitas al psiquiatra también nos dice que trankimazin diazepan

son habituales en los botiquines de nuestras casas beraz

escuché a algún activista decir a algún activista en salud mental decir que precisamente la cordura es abordar

y con dignidad la locura nos toca ponernos a trabajar en ello eskerrik asko eskerrik asko gorrotxategi andrea erantzuteko

existe un plan de salud por el cual trabajamos como gobierno donde también está incorporada la atención a lo que es la salud mental en general

este mismo año traigamos al parlamento un proyecto de ley de salud

relevante una cuestión muy compleja y que los técnicos y los expertos están trabajando sin embargo de la primera intervención

donde nosotros y nosotras precisamente estamos trabajando la afección a la salud mental también como consecuencia de la pandemia le invito a que analice lo que es el programa betirako que ha tenido también su proyección en actos que hemos llevado a efecto en las últimas semanas en todo caso a lo largo de toda la pandemia también ahora han intentado que la acción del gobierno estuviera libre de dos peligros

exceso de catastrofismo y también el exceso de optimismo

en todo caso la situación mejora claramente tenemos motivos para la esperanza y no obstante no debemos bajar la guardia por el momento

trae también estas consecuencias y luchamos contra una pandemia global y estamos viendo por ejemplo el retroceso en el reino unido por la variante india me preocupa el exceso también de catastrofismo y alerto ante la manipulación y las medias verdades las comparaciones sesgadas de datos parciales y puntuales

considerando los datos y la realidad de cada territorio histórico para ser conscientes de la complejidad de la situación en todo caso

explicación contrastada insisto que la afección consecuencia de la pandemia

es algo que nos está preocupando y ocupando creo que tenemos ámbitos para poder trabajar conjuntamente eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna

egun on lehendakari esta última semana ha resultado preocupante seguir las contradicciones y desmarques

el gobierno del señor sánchez ha pretendido imponer medidas de obligado cumplimiento como sabemos medidas sin estado de alarma por mayoría pero sin consenso y con grave impacto

y me alegro por momentos perdóneme que se lo diga se le ponía a usted cara de ayuso que me congratuló pero no hizo nada práctico no lo hizo porque incluso

se encargó de aguar la fuerte reacción inicial de los socialistas vascos y como por ensalmo su gobierno pasó

la deslealtad del señor sánchez al más absoluto comedimiento esta semana ni siquiera acudieron a votar al consejo interterritorial de la salud que es la vía propia

otros se ocuparon de recurrir y la justicia actuó pero todos recordamos

en su gobierno entre el pnv y partido socialista de euskadi y las acusaciones de deslealtad

ahora su partido el partido nacionalista vasco es el que repite las denuncias que hacía yo aquí en esta sesión de control hace quince días que reflejan una crisis notable con su socio
el desleal señor sánchez por eso le pregunto cómo valora la crisis abierta por la deslealtad de sánchez tras conocer las medidas de supuesto obligado cumplimiento eskerrik asko

legebiltzarburu andrea eskerrik asko señor iturgaiz por encima de otras consideraciones

y valoro la capacidad para encontrarlas eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna

organizados al amparo de la constitución del setenta y ocho a la que él es desleal sin duda que haya una crisis de relaciones entre socios de gobierno de este gobierno frankenstein tampoco es objeto de

la inutilidad de esa asociación tan estrecha entre el pnv y el partido socialista obrero español del gobierno vasco y gobierno sánchez inútil en términos de estabilidad o de prosperidad

porque incluso a usted en algún momento le han ninguneado pero no es que lo diga yo es que mire cuando

tumbó las famosas medidas el señor mediavilla volvió a levantar la voz y habló de crisis a las claras hace dos semanas usted quiso escaparse de mi pregunta

en el tav en el ingreso mínimo vital o en sanidad

los mismos que yo le mencionaba y él lo califica como crisis

y ya han puesto sobre la mesa la receta para solucionarla

el señor ortuzar como el propio señor mediavilla apuestan por sacar del cajón el famoso nuevo estatus

ese nuevo espantajo verdadera apología de deslealtad para con la sociedad democrática vasca mi impresión es que

quiere sumar la propia su vieja deslealtad con los vascos con la convivencia entre vascos con el pluralismo y las libertades en el país vasco y me gustaría que lo desmintiera usted señor urkullu que ofreciera garantías de que no van a emprender desde su gobierno caminos a ninguna parte

marca de la casa del señor sánchez que sabrán ustedes reconocer en el espejo catalán la mueca de una sociedad tan dividida y enfrentada como lo fue la vasca con el plan ibarretxe porque su obligación es evitar que la división y la ruptura entre vascos se vuelva a repetir

todo lo que no les convenía a los vascos serán capaces de evitar su propia deslealtad hacia la sociedad vasca con ello los precedentes son malos
tiene ocasión de escribir una página mejor de nuestra historia eskerrik asko iturgaiz jauna

eskerrik asko legebiltzarburu andrea para que las señoras y señores parlamentarios

y la audiencia en general sepa cuál es la pregunta original dirigida a mí es cómo valora la deslealtad del señor sánchez

aprobadas por el consejo interterritorial de salud esta es la pregunta original

la seguridad jurídica como ustedes lo propusieron pero que sigo sin verla efectiva señor iturgaiz esta alternativa no se propició

que ha de pasar a plantear recomendaciones porque la competencia también en materia sanitaria nos corresponde y es cierto que comprometimos no judicializar estas decisiones

del gobierno vasco usted insiste en hablar del partido nacionalista vasco mezclándolo con el gobierno vasco de coalición

de la situación y la búsqueda de acuerdos y mi responsabilidad es defender el autogobierno vasco y todas nuestras capacidades y mi compromiso es no alimentar más de lo necesario la polémica política porque lo prioritario sigue siendo dar una respuesta conjunta y eficaz a la pandemia sanitaria y sus consecuencias usted

con todas las instituciones participantes y presentes en el labi

unidos con un mismo objetivo que es superar cuanto antes esta pandemia que está afectando a todas las comunidades y a todos los países del mundo según la

satisfacción global de la ciudadanía vasca con su vida ha aumentado a pesar de la pandemia

y ahora es el siete coma seis notable esto es también

el bienestar la salud y la vida de las personas beraz

gracias señora presidenta buenos días señor lehendakari señoras y señores consejeros

representantes de los grupos parlamentarios señor lehendakari vox nace en álava

en este parlamento y desde su nacimiento hemos sido objeto de una campaña permanente de acoso y derribo sin precedentes sufrimos

promovido entre otros por bildu y por ustedes partido nacionalista vasco

y las últimas semanas han venido a poner en evidencia que quienes crispan tensan la cuerda y mantienen actitudes fascistas

señor lehendakari cómo piensa abordar su relación con sortu una fuerza política que se niega a condenar la violencia

y función institucional mi relación intenta producirse con todos los grupos parlamentarios en esta cámara por lo tanto con euskal herria bildu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

su propio vicelehendakari primero el señor josu erkoreka dice que sortu sus juventudes

también el señor ramiro gonzález diputado general de álava ha pedido la expulsión de los violentos además se recupera parte de la izquierda

nuestra policía autónoma vasca odio y violencia que nos recuerda a un tiempo pasado un tiempo pasado teñido de sangre

estos comportamientos de ahí que ernai esté ahora en manos de la justicia

pero no dijo qué pasaría si no lo hacía y es un hecho que ni lo hace

alguno de que lo vaya a hacer pero cuál es el papel de ustedes en este juego les dan cobertura desde el parlamento mientras acusan a vox de ser un riesgo para la política el pnv es cómplice

no lo son prefieren callar y cercenar los derechos

ha sido introducir una papeleta de vox en las urnas las palabras lo sostienen todo pero los hechos no

usted ha contribuido a que el señor otegi sea considerado un hombre de paz a sabiendas

ha sido de boquilla una falsa renuncia que es el aval que además utilizan para justificar la política de acercamientos y el plan de resocialización de presos la realidad es que la violencia sigue siendo parte

que hacen un cordón antidemocrático a un partido como vox que es completamente democrático mientras pactan con bildu sí pactan pactan con bildu y además se fotografían con bildu

señor lehendakari termino diciendo el que calla otorga eskerrik asko martínez andrea lehendakari jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzarburu andrea señora martínez le repito la respuesta de mi intervención anterior que desde el ejercicio de mi responsabilidad y mi función institucional

representados en esta cámara y hay un grupo que es euskal herria bildu y dentro de ese grupo ha habido voces también en relación con las condenas sobre las pintadas que han sido diferentes

lo que es el respeto a una representación política en este parlamento en un grupo parlamentario eh bildu

cosa que no ha dicho aquí en su intervención en todo caso por lo tanto mi relación será con eh bildu de la misma forma que con vox insisto a pesar

mire la apuesta de este gobierno coincidente con una gran mayoría de esta cámara y de la sociedad vasca es una apuesta clara y decidida por la convivencia basada en el respeto a todos los derechos humanos

y sentimiento como ejercicio de verdadera democracia abordo el objetivo de la convivencia con total convicción y determinación remarcando la sinrazón de la violencia y el terrorismo

forma parte de nuestro ideario es una prioridad en nuestra responsabilidad pública

uno la deslegitimación radical de la sinrazón del terrorismo y de toda expresión de violencia y desde la década de los sesenta del siglo pasado hasta hace diez años

ha supuesto la más grave conculcación del derecho a la vida y a la democracia durante medio siglo de historia de este país este reconocimiento expreso explícito sin ambages no debe ocultar que euskadi fue también objeto del terrorismo de extrema derecha y de otras violaciones de derechos por motivación política

no solo el reconocimiento del daño causado por el terrorismo exige una interpelación en términos éticos

una doble conclusión fue injusto y nunca más dos reconocimiento legal e institucional social simbólico y moral de las víctimas

y debemos a las víctimas el reconocimiento moral más radical profundo y sincero porque su padecimiento fue injusto

una memoria abierta inclusiva crítica y ética tejida a través de la mirada de las víctimas una memoria que incluya todas las miradas todos los hechos todas las experiencias una memoria que ponga en valor el compromiso de una gran parte de los hombres y mujeres de este país

y cuatro convivencia convivir en la diversidad convivir entre quienes pensamos y sentimos diferente

respetar reconocer empatizar dialogar compartir quiere decir proteger y garantizar de forma efectiva los derechos de todas las personas estos son los principios en los que estoy seguro se reconocen una inmensa mayoría de los vascos y vascas son las bases sobre las que queremos construir el presente y el futuro unas bases
democráticas éticas para todas y todos y para siempre eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako zazpigarren puntua galdera

es únicamente la creación de una ventanilla única cuando hace un año se produjo el acuerdo para la transferencia del ingreso mínimo vital para la encomienda de la gestión nosotras ya dijimos que era un acuerdo de mínimos para evitar el caos que

si se evitó ese caos pero es un acuerdo de mínimos gure sistema propioa trinkotzeko zabaltzeko eta indartzeko aukera leiho bezala ikusten dugu ingreso minimo vitalaren transferentzia pero lo propuesto por el ministro escrivá desde luego no permita esa integración

y además lejos de eso subordina totalmente

la rgi al ingreso mínimo vital y diría que es un torpedo

en su propuesta de reforma de la renta de garantía de ingresos une kritiko hau baliatu behar dugu gure sistemaren diseinu berri bati

eta prestazio guztiena ere porque esto no va solamente del ingreso mínimo vital

es que esta transferencia debería ser la antesala el previo a la transferencia del resto de políticas pasivas de empleo y de la seguridad social en general

pues es bastante preocupante y desde luego nosotras cuarenta años después ni queremos ni vamos a admitir

garantías de que la transferencia se produce en su totalidad sin más dilación y eso es lo que le pedimos nosotras trabajaremos en esa dirección pero eso es lo que le pedimos tanto a usted como a este gobierno que la transferencia se produzca en su totalidad

porque se lo he trasladado en numerosas ocasiones en las reuniones que hemos mantenido desde que tomé posesión como consejera de trabajo y empleo que solo nos planteamos la transferencia íntegra por qué pues porque primero tenemos un sistema muy completo de protección social

estamos en una reforma de ese sistema que cuenta como parte del mismo y de integrarse en el sistema por qué porque al final para dar un buen servicio a los ciudadanos necesitamos

sino que reciba la prestación que necesita para llevar

nosotros desde el primer momento hemos mantenido comisiones de trabajo porque yo cuando tomé posesión teníamos la encomienda de gestión había que hacer una comisión bilateral la pusimos en marcha

sea una realidad para todos los vascos y vascas que tienen derecho

sea materializable en un tiempo breve la propuesta mandada por el ministerio evidentemente no es satisfactoria lo consideramos un punto de partida a partir del cual empezar a trabajar y no contemplamos

una sucursal de otra administración en absoluto como le he dicho en el primer turno si la transferencia no se materializara de una manera íntegra evidentemente no estaríamos gestionando el imv pero nosotros lo que tenemos claro es que

tiene que continuar trabajándose en estas comisiones de seguimiento a diferentes niveles desde mi departamento con el ministerio en lo que tiene que ver con el trasvase entre rgi e imv y en lo que tiene que ver en una comisión

para la transferencia por lo tanto nosotros no vamos a asumir un traspaso que no conlleve la gestión completa e íntegra del ingreso mínimo vital en lo que tiene que ver en la parte del reconocimiento y en lo que tiene que ver y esa es una posición compartida del conjunto del gobierno vasco lehendakari la consejera de gobernanza y yo misma que soy la que tengo que gestionarlo nosotros
en euskadi y ya lo hemos dicho en muchas ocasiones hemos sido capaces de crear un sistema de garantía eskerrik asko mendia andrea

buenos días señorías interpelamos hoy al gobierno sobre un asunto de actualidad de máxima actualidad diría yo que afecta y preocupa a todos los ciudadanos vascos

el elevado precio de la electricidad como todos sabemos el precio de la electricidad afecta sobre todo a las familias con menos recursos económicos y a las empresas

pagar la luz les supone un problema que afecta a su vida diaria

o de calentamiento de agua o a no poder utilizar electrodomésticos básicos para la vida diaria y en la mayoría de las empresas la electricidad es el segundo coste más importante después de los costes salariales y en las empresas intensivas

supone un encarecimiento de los costes que les dificulta de forma crítica la competitividad en precios y es que tenemos el precio

más caro de europa por detrás solo por detrás de irlanda italia y eslovenia

es un veintiuno coma cuatro por ciento más cara que en francia o un veinticinco coma ocho por ciento más cara que en alemania

teniendo en cuenta que el cuarenta y seis por ciento de las exportaciones vascas son a países de la unión europea

una empresa vasca en europa con uno de los costes energéticos más altos y la realidad es que lo hacen lo consiguen a pesar de todo

el esfuerzo que hacen para compensar de otra manera esos costes añadidos por si fuera poco

se produjo a las ocho de la mañana con un precio de noventa euros megavatio hora quedándose

euros megavatio hora durante un día un año antes el lunes ocho de junio

y hoy creo que andábamos parecidos estamos sufriendo los precios de la electricidad más caros de los últimos años

borrasca filomena en enero que provocó en este caso sí de forma coyuntural un incremento durante dos semanas

de acuerdo con el simulador de la factura de la electricidad recogido en la web de la comisión nacional del mercado de la competencia

a una potencia de tres coma cuarenta y cinco kilovatios se ha incrementado en el último año un cuarenta y cinco coma uno por ciento qué familia

de un cuarenta y cinco por ciento y los principales componentes de este incremento

son dos el incremento por una parte de los precios de los derechos de emisión de ce o dos

en el último año y el encarecimiento del precio del gas que se consume en las centrales de ciclo combinado que está en máximos de tres años ambas razones confirman que el incremento que estamos sufriendo ahora de precios de la electricidad no es un hecho coyuntural

sin embargo ambos dos factores derechos de emisión de ce o dos y precio del gas

sesenta y siete coma veintiuno euros fue el cuarto más caro de la unión europea solo por detrás de irlanda noventa y seis coma setenta y tres italia con sesenta y nueve coma noventa y uno y eslovenia

siendo un veinticinco coma ocho por ciento más caro que en alemania y un veintiuno coma cuatro por ciento más caro que en francia directos competidores de muchas de nuestras empresas exportadoras esta subida del precio de la electricidad se mezcla ahora con las nuevas franjas de tarifación

ni se han implementado en el mejor momento y en vez de una adecuada explicación lo que tenemos por parte del gobierno es una serie de recomendaciones

tanto a los consumidores vulnerables como autónomos teletrabajadores y empresas

un cuarenta y cinco por ciento no se le puede recomendar que planche de madrugada

y a esto se le añade que españa está entre los países europeos que aplican un iva más alto a la luz

en alemania es un diecinueve por ciento en italia un diez por ciento

un cinco coma cinco por ciento y no olvidemos que adicionalmente la electricidad está penalizada en españa con el impuesto de la electricidad que añade otro cinco coma once por ciento y que según un portavoz de la ocu está destinado a financiar a las comunidades autónomas y es que parte del problema

en españa está dominado por un oligopolio en el que tres grandes empresas controlan el sesenta por ciento de las ofertas de las subastas

y por qué nos habla de un tema que no afecta o que no depende directamente de euskadi somos conscientes de que este es un tema que no depende directamente del gobierno vasco ni que está bajo nuestro control en este parlamento pero lo traemos aquí

porque tenemos en esta cámara y en este gobierno a los dos mismos partidos que están gobernando en madrid y que por tanto son responsables de esta situación que tanto denunciaban cuando estaba en la oposición en segundo lugar

podrían exigir a su socio en madrid que moviera ficha al respecto y no lo están haciendo

porque es muy relevante afecta a nuestros colectivos vulnerables afecta a nuestras empresas a la competitividad

y deberían ocuparle y preocuparle intensamente pero es que además según el informe anual de red eléctrica

solo el dieciséis por ciento y esto nos hace dependientes del gas como ya se ha dicho aquí muchas veces en euskadi estamos pagando una política energética que durante años no ha sido no ha ido alineada con las políticas verdes

apuesta que hoy está realizando el gobierno vasco en energías renovables pero hasta llegar a la red

que fíjese a treinta y uno de diciembre del dos mil diecinueve tenían en ciento cincuenta megavatios instalados más que nosotros

y son muchas las cosas que se pueden hacer desde aquí para paliar esta situación medidas a corto

necesitamos poner sobre el papel con inversiones concretas y fechas de ejecución las iniciativas que se incluyen en la ley de cambio climático y sostenibilidad que son bastantes pero a corto plazo tenemos un problema porque no hemos hecho los deberes y nosotros pensamos que una buena medida para paliar el desmesurado incremento del precio de la luz es reducir el iva

pero creemos que pueden insistir en madrid para conseguirlo como hacen con otros temas y mientras tanto puede compensar esta subida con ayudas cheques o bonos

de industrias estratégicas de pymes o de los colectivos vulnerables por eso nos ha parecido relevante hoy preguntarle al gobierno vasco qué iniciativas ha puesto en marcha el gobierno para

en usuarios vulnerables autónomos pymes y empresas muchas gracias eskerrik asko gil jauna erantzuteko tapia andrea zurea da hitza

internacional que en este momento está provocando que los precios energéticos sean altos que afectan al petróleo al gas natural a las emisiones de ce o dos

en mercados energéticos en todas partes el gobierno vasco usted lo decía carece de competencias en materia de regulación de mercados y de precios energéticos por tanto esas actuaciones corresponden tanto al ministerio

y desde euskadi y en virtud de nuestro estatuto de autonomía nuestras competencias en esta materia se circunscriben al desarrollo y ejecución de la normativa estatal básica

sin extenderme en exceso una serie de normativa y voy a hacer referencia a dos concretamente que recientemente hemos aprobado por una parte

para optimizar el consumo de las empresas del país vasco la ley cuatro barra dos mil diecinueve de veintiuno de febrero o el decreto doscientos cincuenta y cuatro barra dos mil veinte de diciembre

en referencia a auditorías energéticas y la mejora de la eficiencia energética en empresas y perdóneme que le recuerde también

la colaboración con las empresas y su eficiencia energética y otra que establezcamos ayudas directas que desde luego son contrarias a competencia como usted lo sabe y que directamente serían consideradas como ayudas de estado

más allá de estar limitado insisto por ese poder normativo que se encuentra en el estado velamos por los intereses de la sociedad y de las empresas vascas

puesto que en esta cámara se han debatido y se han implementado y la consejera está aquí presente ayudas a la ciudadanía en situación de pobreza energética y por tanto se han puesto en marcha

y estableciendo medidas e implementando actuaciones mucho tiempo no hoy en relación a los sectores industriales qué es lo que me compete

muchos años trabajando con actuaciones dirigidas a reducir la factura energética a través del fomento de ayudas de ahorro energético de eficiencia

de edificios estamos tratando de mejorar aprovecho para también comentar medidas establecidas en cuanto a autoconsumo que permiten paliar un poco los costes energéticos

en el público y que se han implementado desde hace mucho tiempo por tanto insisto no es reivindicar hoy es actuar desde hace mucho tiempo y le quiero recordar desde luego desde que yo tomé posesión de mi cargo de consejera la primera vez en el año dos mil trece en septiembre de dos mil trece me reuní con el ministerio

y recientemente con muchísimas actuaciones intermedias con la ministra reyes maroto pero en el año dos mil trece

y trabajando una serie de medidas haciendo propuestas no sé dónde estaban ustedes y desde dos mil trece hasta ahora tampoco les he visto en ningún sitio la competitividad en la industria desde luego gira en torno a todo este tipo de actuaciones y la política energética tiene que estar

no la haremos de una forma adecuada y el diferencial de costes usted hacía referencia a muchísimos datos son ciertos pero sobre todo esos costes están basados

estructurales y los costes regulados son allí donde deberíamos enfocarnos porque hemos hecho muchísimas propuestas bien valoradas trabajadas con el sector e insisto

y les espero y espero que nos acompañen además hemos puesto en marcha además modificaciones normativas

con el objetivo de que una discriminación que se estaba produciendo en nuestra industria relativa a los peajes eléctricos también fuera paliada con un efecto positivo de cien millónes de euros para la industria vasca

por tanto además de la crisis derivada de la pandemia que hace que los costes en este momento se encuentren como le decía internacionalmente

existen una serie de elementos y de regulaciones en el estado como son el estatuto de consumidores electro intensivos el fondo de sostenibilidad del sistema eléctrico el nuevo calendario tarifario en suma una serie de aspectos normativos que no responden a las expectativas de la industria y que tenemos que tratar de modificar

suponen una merma en su competitividad y el pasado tres de marzo

electro intensiva de este país para volver a presentar ante

de acuerdo con sus necesidades tanto en lo que corresponde a la parte de costes energéticos como a los de emisiones de ce o dos es un debate no nuevo en el que vamos a estar siempre presentes y desde luego un debate que se está produciendo entre dos ministerios ministerio de industria y ministerio

desde luego hay veces que las posiciones no son iguales y que tenemos la obligación de hacer propuestas

que ustedes también aunque sea un poquito tarde se incorporen a estas actuaciones a estas exigencias y al trabajo como usted decía en madrid que es donde corresponde desde el gobierno vasco las actuaciones en cuanto a eficiencia energética y ayuda

a la edificación y desde luego esas actuaciones a las personas más desfavorecidas las llevamos poniendo en marcha desde hace muchos años eskerrik asko

y me consta su preocupación por el tema su respuesta lo que me viene a decir es que el asunto es coyuntural no no es coyuntural

el segundo es no tenemos competencias y

que decía lo que no me compete no me incumbe y luego me habla usted de la normativa aprobada

en estos últimos meses por supuesto que nosotros estamos haciendo lo que tenemos que hacer en el congreso de diputados y si mira usted lo que hemos presentado allí verá usted que está absolutamente en esta línea pero

sobre el tema seamos los que menos potencia tenemos instalada mire el precio de la electricidad

bastante más yo creo que lo que se está haciendo no es suficiente y creo que en la situación actual es evidente que lo refleja

y es un asunto que está frenando de forma importante el verdadero desarrollo de euskadi pero este es el verdadero desarrollo de euskadi no el raca raca identitario de quítate tú para ponerme yo que cada vez interesa a menos gente

de euskadi porque nuestras empresas tienen verdaderas dificultades para competir por el elevado coste energético

porque nuestros ciudadanos tienen dificultades para pagar la educación el dentista o la calefacción y

responsabilidad del gobierno y además tienen una responsabilidad doble

socios del gobierno de españa en ese sentido yo creo que merece la pena que todos asumamos nuestras responsabilidades y que especialmente el gobierno vasco haga un esfuerzo especial

que ayuden a resolver la situación actual que es específicamente alta que es específicamente preocupante que no nos valen seguramente las medidas que tenemos delante porque no son suficientes tenemos un problema coyuntural

por tanto cuenten con nuestra colaboración para ello muchas gracias eskerrik asko gil jauna tapia andrea

de profesoras se me están terminando porque se ve que no me he conseguido explicar muy bien he hablado de que la coyuntura actual ha empeorado la situación pero desde luego no es nuevo y las medidas las venimos trabajando insisto desde luego desde que yo estoy en diciembre de dos mil doce hemos ido poniendo

trabajando en ellas implementando actuaciones mejorando insisto eficiencia energética ayudando a las personas más desfavorecidas son actuaciones ya implementadas no por coyuntura en segundo lugar actuaciones y competencias efectivamente

insisto hemos puesto en marcha diferentes medidas y las seguimos estableciendo

a las personas más desfavorecidas y veremos qué ocurre ahora con los nuevos precios que se han establecido como consecuencia de la nueva regulación

adaptadas a la situación y le he dicho la reunión que mantuvimos el tres de marzo con las empresas electrointensivas desde luego fue para analizar el tema energético y para analizar

suficientemente actual como para que lo tengamos en cuenta medidas concretas para mejorar la situación

pagado entonces y se tenían que haber pagado ahora por tanto en marcha en cuanto a las renovables me encantaría que usted se pusiera de acuerdo con su compañera de grupo con la señora larrea porque últimamente creo que lo hemos visto en esta tribuna

parques fotovoltaicos que en este momento nos ayudarían a mejorar mucho nuestra capacidad y nuestro mix energético en euskadi espero que a partir de ahora lo apoyen una vez que se hayan puesto ustedes de acuerdo eskerrik asko

zurea da hitza sí gracias presidenta buenos días consejeras señorías bien señora tapia
vamos a hablar de álava y de las inversiones de sprilur bueno de la falta de inversiones de sprilur

y se constituyó en el noventa y cinco con vocación de contribuir al impulso y mejora

un territorio histórico álava sufre de la falta de esfuerzo de sprilur en estos últimos años mire las inversiones realizadas por la sociedad sprilur sa en el territorio de álava fueron de cinco

en dos mil diecinueve y cero euros en dos mil veinte sobre un total de veintiséis coma cinco millónes de euros

por ciento álava cuarenta coma setenta y tres por ciento bizkaia el cincuenta y nueve coma veinticuatro por ciento gipuzkoa

a la vista de las inversiones de sprilur señora consejera los ejercicios dos mil diecinueve y dos mil veinte

cuál es la razón señora consejera de la clamorosa falta de inversiones en el territorio histórico de álava por parte

señor barrio en primer lugar señalar que esta administración cuando actúa en cualquiera de los territorios históricos no actúa únicamente a través de sus herramientas

e incluso a otras medidas como puede ocurrir

en el parque tecnológico de araba y todas las actuaciones asociadas a jundiz

de la búsqueda de suelo y la atracción de empresas en el ámbito

directamente en primer lugar señalar por qué ha ocurrido esto tenemos un proyecto o dos proyectos muy relevantes

en iruña de oca que estarían unidos por las necesidades de movimiento de tierras que requieren

bastante parados como consecuencia de que necesitaban un informe de la confederación hidrográfica para que pudiéramos tomar medidas en cuestión de inundabilidades

el ayuntamiento de gasteiz que es el competente debería tomar la decisión de implementar esa solución hidráulica con la tramitación urbanística correspondiente

pueda llevarse a cabo esa gran actuación con una inversión millónaria y que desde luego nos permitiría tener suelo suficiente

señora tapia deberá aceptar que algo ha fallado algo

los objetivos que sprilur tiene en relación con la dinamización

además de eso que me cuenta hay más necesidades señora tapia hay más necesidades sinceramente esta es la historia de una discriminación

en estímulo empresarial en el país vasco un tema del que están preocupados este grupo por supuesto porque lo tiene que estar y tiene que preguntarle por ello pero entre otros la cámara de comercio de álava

que también consideran prioritario anticipar la oferta de terrenos para dar respuesta urgente a las necesidades de empresas

que recordemos tiene como objetivo y función contribuir a la mejora e impulso del tejido empresarial en álava y ese objetivo señora consejera ha fallado en estos años porque nos hemos referido a los años dos mil diecinueve y dos mil veinte

pero tengo que decirle que en el año dos mil diecisiete y dos mil dieciocho es decir los dos años anteriores las inversiones han sido también clamorosas en ese sentido ha sido el cero coma seis por ciento de las inversiones de sprilur los destinados a álava es decir el cero coma seis por ciento

no tiene sentido señora tapia no tiene sentido estratégico cuatro años de cero inversión en álava

y hay muchas necesidades y está bien claro que ese es el asunto por el que usted debe de responder y además las inversiones anteriores a esos años

muy por debajo del peso específico y económico de álava en relación con la empresa y con la industria y con la economía este es un agravio comparativo

que apueste también por álava y hace tiempo que carecemos de ella desde el gobierno vasco por la tendencia en el tiempo aquí

eskerrik asko barrio jauna tapia andrea zurea da hitza le reitero señor barrio que
efectivamente en álava también hace falta suelo y grandes parcelas para poner en marcha actuaciones dispone de diferentes posibilidades de actuación con el presupuesto correspondiente y le repito

en subillabide y también en legutio ocurre que además como usted sabe además de disponer de

autorizaciones municipales y ahí tienen ustedes mucho que decir y mucho que hacer por tanto sprilur y el gobierno vasco están dispuestos a activar esas tres inversiones desde luego que son millónarias pero

pero no obstante sí quiero señalar que además las actuaciones llevadas a cabo en arasur logísticas en jundiz también logísticas con su correspondiente

importantes y también requerimos poder ampliar

araba el parque tecnológico de miñano para poder absorber diferentes actuaciones una vez más requerimos autorización municipal y ustedes tienen muchísimo que decir por tanto

tecnológicos y todas aquellas sociedades en las que participamos dispuestos a colaborar a trabajar

requerimos que desde luego desde la parte municipal puedan ser actuaciones que sean bien consideradas para poderlas llevar a cabo esto es trabajo de todos no solo

además de esas inversiones por ejemplo todo el edificio de azucarera ha sido puesto en marcha renovado para actuaciones necesarias dentro de lo que es el ámbito de vitoria gasteiz

por un lado están interesados por el proyecto artístico pero también están preocupadas por la gestión que hace el ayuntamiento y es que justificar una obra con un sobrecoste que va más allá de los cinco millónes de euros necesita de toda la capacidad de marketing del gobierno vasco

su departamento aparece como colaborador de este proyecto desconocemos si han puesto fondos o en qué se concreta dicha colaboración

por los impactos ambientales y por el sobrecoste que está suponiendo por ello desde nuestro grupo parlamentario nos gustaría saber su opinión

los impactos económicos y medioambientales que está teniendo esta obra

señor angulo el departamento de desarrollo económico sostenibilidad y medio ambiente ha participado y colaborado económicamente exclusivamente

sábado de la escultura de cristina iglesias en el faro de la isla de santa clara el evento se titulaba la costa rocosa geología ecología y escultura tuvo lugar los días tres y cuatro de junio y se incluía

upv ehu y la fundación bbva la participación en este simposio sobre arte y medio ambiente se redujo a una aportación de quince mil euros que fue ejecutada por nuestra sociedad pública de gestión ambiental ihobe

nuestro firme apoyo a este tipo de proyectos donde se pone en valor el respeto medioambiental y al mismo tiempo se fomenta un espacio

esa ha sido nuestra actuación concreta de apoyo al proyecto hondalea eskerrik asko eskerrik asko tapia andrea angulo jauna zurea da hitza muchas gracias consejera pues en nuestra opinión
en esta obra hay numerosos aspectos que deberían ser al menos investigados

hondalea es un ejemplo de la política cultural del pnv una política basada en megaobras con constructoras consultoras afines y que con ello se llevan unos jugosos contratos y unos pingües beneficios hondalea

y no solo lo dice nuestro grupo parlamentario sino que también la secretaría y el departamento de intervención del ayuntamiento de donosti han advertido en reiteradas ocasiones de la ilegalidad respecto a los contratistas y de los continuos incrementos en los costes de obra que se licitó por uno coma cinco millónes y que están superando los cinco millónes tanto es así que desde el sindicato lab del ayuntamiento de donosti

las irregularidades que se dan desde el mismo comienzo pues todavía no se han encontrado ninguna resolución que adjudicara a lks en el dos mil dieciocho la redacción del proyecto

fue un contrato que se adjudicó directamente al ser un contrato menor y como este ha habido varios contratos menores y negociados sin publicidad procedimientos opacos y excesivamente usados por el pnv

nos llama mucho la atención que el actual director del departamento de proyectos y obras del ayuntamiento donostiarra alfonso vázquez hubiera trabajado con la constructora moyua

también cómo la constructora moyua ha ido incrementando los costes de la obra y

se tengan que rehacer las licitaciones cómo es posible que de un millón se pase a cinco millónes y a nadie le sorprenda y por supuesto

de esta intervención el poco respeto que se ha mostrado por el espacio protegido

el impacto que puede causar la masificación de la isla por el turismo ya ha sido un asunto denunciado por las asociaciones ecologistas

y esperamos que este se realice bastante rápidamente por todas estas causas

ha solicitado una auditoría en el ayuntamiento de donosti para investigar este contrato con tantas sombras y tantos sobrecostes la auditoría y la fiscalía nos indicarán la gravedad de estas irregularidades
necesario pedir algún tipo de responsabilidad por este despilfarro del dinero público muchas gracias señora presidenta señora consejera eskerrik asko

el lugar en el que tiene que celebrarse este debate es precisamente en el ayuntamiento de donostia porque por un momento he pensado que estábamos constituidos

pero creo que no usted me ha preguntado cuál ha sido nuestro papel como departamento y creo que se lo he comentado

ambiental promovidas por nuestro departamento y en ese sentido hemos colaborado con ese simposio que se ha celebrado e insisto creemos que en este caso la cultura la geología y la biología han sido tratados de forma experta y de forma internacional eso es nuestra contribución y desde luego lo que queremos trabajar en pro insisto de la sensibilización a partir de ahí todo lo referente

y muy variadas las razones que han llevado a una cada vez más menguante recaudación de impuestos procedentes de los beneficios de las empresas o de la acumulación del capital y en cambio no ha dejado de subir el peso de la recaudación proveniente de los ingresos laborales o de los impuestos

en la que como todos bien saben pagamos todos por igual indistintamente de nuestra situación económica muchas voces venimos reclamando largamente

en pos de la equidad de la progresividad y en contra de la brecha social una política fiscal y tributaria suficiente para alimentar las políticas públicas tan necesarias para afrontar los retos tanto sociales como económicos o como que debemos afrontar en este nuevo siglo venimos trabajando por desmontar mitos que el neoliberalismo ha impuesto como mantras en los últimos años

y no realidades porque bajar impuestos no incrementa la recaudación tributaria porque reducir impuestos a las empresas no trae automáticamente más empleo

lo que han supuesto es que la recaudación de las haciendas esté lastrada por la elusión fiscal han supuesto una brutal caída de la contribución de las grandes corporaciones y una más que irrelevante contribución

fortunas y ante esto ha tenido que llegar lamentablemente una pandemia para que algunas voces del establishment cambien el tono

del refuerzo de impuestos como el patrimonio y sucesiones o de un impuesto mínimo global

hemos escuchado por ejemplo al fmi recomendar a las economías avanzadas poner freno a la erosión fiscal de los últimos años

la renta el patrimonio sucesiones y además eliminar lagunas fiscales le hemos escuchado proponer un impuesto sobre el exceso de beneficios de las empresas y sobre las rentas más altas para que aquellos a los que mejor les ha ido durante la pandemia porque ha habido a quien le ha ido bastante mejor hagan una contribución fiscal especial

cuya medida principal entre otras muchas es aplicar un impuesto mínimo global

la presidencia del consejo de la unión europea y el parlamento europeo han alcanzado un principio de acuerdo sobre la directiva que obligará a las multinacionales que operan en el mercado comunitario

o jurisdicciones consideradas por bruselas como paraísos fiscales

printzipio komunen aldaketa sakona egin dute estatuen arteko zerga diru bilketan la pandemia y el impacto que esta ha generado

y no se puede obviar el cambio político producido en estados unidos que a su vez provocó un cambio de posición en el país en distintas materias

y antes de la era de trump estados unidos también venía apoyando por lo tanto este proceso de análisis y reflexión ya se había iniciado mucho antes de la pandemia

un plan de acción integral tremendamente ambicioso desarrollado en el ámbito de la ocde y encaminado a reestablecer la confianza en el sistema tributario internacional

donde se desarrollan las actividades económicas generadoras de valor premisa básica que impera en el ámbito de la fiscalidad internacional actual y que nosotros apoyamos apoyamos con convicción dicho plan del ge veinte sobre la erosión de las bases imponibles y el traslado

reforzar la coherencia de las normas fiscales del impuesto sobre sociedades a nivel internacional realinear la fiscalidad con la actividad económica real

de las rentas y mejorar la transparencia de forma que la información sobre las multinacionales y su tributación pudiera ser compartida entre las distintas administraciones

la ocde y la unión europea identificaron también sus propuestas

ya que la digitalización facilita la capacidad de las empresas y consumidores de adquirir servicios y bienes intangibles de proveedores situados en cualquier parte del mundo

para incorporar el régimen de ventanilla única para las prestaciones de servicios o ventas de bienes a distancia a consumidores a partir de julio del veintiuno dentro de nada

todas y cada una de las medidas adoptadas ya han sido incorporadas a la normativa tributaria vasca salvo la directiva que lo será en las próximas semanas la incorporación de este nuevo régimen especial exige realizar diversos acuerdos adicionales

para poder alcanzar un acuerdo en la comisión mixta del concierto

del pacto verde la comisión presentará propuestas para asegurar que la fiscalidad respalde el objetivo de la unión europea de alcanzar la neutralidad climática en dos mil cincuenta buscando una tributación más justa más ecológica y más acorde con la economía moderna y en este sentido se espera una modificación de la directiva sobre fiscalidad de la energía y del mecanismo de ajuste en frontera por emisiones de carbono en el contexto del paquete fit for cincuenta y cinco y del pacto verde europeo

la comunicación de este mismo mayo sobre la fiscalidad de las empresas para el siglo veintiuno para propiciar un sistema de tributación empresarial sólido eficiente y justo en la unión europea por el que se pretende establecer una estrategia

y garantizar que haya suficientes ingresos públicos en los próximos años muchas propuestas y mucho trabajo por delante trabajo que desde nuestras instituciones vascas

entre todos estos trabajos a los que hacemos seguimiento parece que finalmente hay uno que va a obtener los consensos necesarios para salir adelante

renovaba el compromiso de hacer frente a los desafíos fiscales derivados de la digitalización de la economía del plan

el enfoque basado en dos pilares el pilar uno pretende establecer nuevas normas sobre el lugar en el que se deberían pagar los impuestos normas sobre el nexo

potestades tributarias entre países donde el objetivo es garantizar que las empresas multinacionales

en el que operan de manera sostenida y significativa aunque no tenga presencia física

un impuesto mínimo mundial y así la semana pasada se alcanzó un innovador acuerdo suscrito por los ministros de finanzas del ge siete relativo a los elementos esenciales de la reforma fiscal internacional

los retos en materia tributaria de la digitalización y también de la globalización de la economía pero todavía queda mucho trabajo por hacer declaraban los firmantes del acuerdo esta decisión da un valioso impulso a los futuros debates entre los ciento treinta y nueve países y jurisdicciones del marco inclusivo

en el cual exigimos seguimos en busca de un acuerdo final que garantice que las empresas multinacionales paguen

el porcentaje justo de impuestos que les corresponde desde el gobierno vasco compartimos con estos organismos internacionales que la forma de actuar

ni políticamente ni económicamente y que por lo tanto deben tributar su parte correspondiente de impuestos allí donde generan valor también en euskadi por supuesto

aún de concertar que los gobiernos hayan elegido la coordinación en vez de la competición en la fiscalidad de las grandes multinacionales creemos que es bueno lo aplaudimos sin embargo y para finalizar no podemos negar las dificultades que suponen para euskadi no poder participar de una forma directa en esos ámbitos

el régimen tributario y financiero del concierto económico es un sistema fiscal integral no solo conocido sino también mediante sentencia del tribunal de justicia de la unión europea como un sistema fiscal de autonomía financiera para establecer y regular su propio régimen tributario de acuerdo a lo establecido en el concierto económico sin embargo y a pesar de que el acuerdo de la comisión mixta de concierto económico del año dos mil diez sobre la participación

supuso un avance en nuestra presencia en los foros fiscales internacionales y de verdad que vamos a esos foros y tratamos de sacar provecho esta no es suficiente y no nos podemos desde luego conformar con esta situación es necesario que las instituciones vascas puedan participar también en aquellos otros foros internacionales

el debate fiscal no podemos ser ajenos al debate fiscal y tenemos que estar en todas las instituciones sean cuales sean y estén donde estén que se traten las cuestiones fiscales

de concierto y esperamos que poco a poco vayamos consiguiendo

en esa guerra de participemos en otros foros internacionales

y lo hemos defendido muchas veces pero volviendo a mi interpelación me ha hecho

a la tributación de las grandes corporaciones que es verdad que yo lo mencionaba

sobre la renta patrimonio sucesiones eliminación de lagunas fiscales etcétera porque eso también está sobre la mesa la tasa covid está sobre la mesa señor consejero y usted lo sabe tan bien como yo y no solo porque lo haya puesto el fondo monetario internacional que la ha puesto

ya que no escucharon la propuesta que euskal herria bildu puso encima de la mesa en esta cámara pero usted sabe que eso está encima de la mesa porque sabiendo

de las grandes corporaciones la elusión de las bases imponibles ya sé que viene de atrás evidentemente es un debate abierto en la ocde hace muchísimos años y que la pandemia ha acelerado un poquito

la fuerza ahorca al final y entonces pues al final se ha acelerado pero la realidad es que

y ahí más allá de participar en los debates internacionales que es cierto que deberíamos de participar ahí también es donde las instituciones vascas tienen mucho que decir tienen mucho que decir porque no puede ser que estemos en la situación en la que estamos que ustedes estén anunciando grandes inversiones de los próximos y que todo lo fiemos a que el sistema tributario actual recoja lo que recoja y al endeudamiento que es útil claro que lo es lo hemos hablado muchas veces usted y yo útil pero hay que controlarlo y aquí

de los impuestos de la política fiscal hoy más pronto que tarde porque si dejamos otra vez el debate de la política fiscal para cuando vengan tiempos mejores

y nunca se sientan ustedes hablar de la política fiscal me ha hablado usted también de la tributación de economía digital que es cierto

esperando no sé si están esperando a que otros actúen y luego concertar impuestos o qué porque aquí también podríamos hacer cosas y usted lo sabe señor consejero y recientemente se ha negado un impuesto en esta cámara cuando se podrían

incluso en esta cámara haber hecho un nuevo impuesto insisto señor consejero

que hay muchos debates abiertos sobre ese mínimo que si debería ser superior ser superior y nosotros abogamos por ello como aboga también el observatorio europeo sobre impuestos de reciente creación que también usted conoce sus informes

señor consejero los impuestos que están en el día a día de la ciudadanía incluso la tasa covid que le estaba comentando es que se han negado a hacer un impuesto especial

lo ha puesto encima de la mesa señor consejero entonces si no queremos tener

es básico tener medios para hacer políticas públicas tengamos medios

podemos hacerlo y no esperemos única y exclusivamente a estas grandes decisiones internacionales que evidentemente son importantes

nuevas vías de recaudación y vamos a estar y tenemos que estar ahí

pero hasta que llegue eso que parece que tardará porque ya llevan bastantes años debatiéndose en muchas cosas

hay otros temas otros impuestos que se deben de tratar se deben de tocar

y yo insisto lo hemos dicho muchas veces señor consejero estamos abiertas abiertos a sentarnos y a hablar y a dialogar pero lo que no puede ser

otra vez digamos no hay más no se puede hacer más no puede ser

y ahora mismo hay un debate abierto a nivel mundial sobre los impuestos hay un debate abierto a nivel mundial sobre los impuestos mucho más allá

sobre toda la tributación y ese debate tendríamos que trasladarlo aquí y tendríamos que actuar ya

señora pinedo usted me ha interpelado sobre la nueva estrategia europea y mundial en relación al sistema

reflexión internacional es absolutamente importante

impulso internacional en muchas de las medidas fiscales al menos

y esta revisión internacional que va a forzar la revisión en todos los ámbitos en todos los estados y en todos esos ámbitos donde hay competencia de la fiscalidad y en euskadi también yo creo que nos va

nuevas pautas va a haber nuevas medidas decisiones que va incluso que modificar modificar el concierto económico y ver en esta nueva realidad fiscal cómo vamos a tener que redefinir si es que hay que hacerlo el concierto y cómo vamos a tener que actuar porque nuestras haciendas que son y recauden todo lo que tienen que recaudar de manera integral en ese sentido pero

de modificar el sistema tributario en estos momentos he dicho que no es el momento yo creo que es

en lugar de subir impuestos aumentemos la inversión y el gasto público utilizando deuda pública yo creo que eso aparte de ser lo más keynesiano me parece

pero en todo caso esa reflexión y esa necesidad de reflexión

además en el marco de esta reflexión a nivel europeo y a nivel mundial diría yo yo creo que se tiene que seguir haciendo precisamente para alcanzar un sistema tributario que nos permita como decía usted al principio que es muy importante financiar las políticas públicas que como país queremos desarrollar a lo largo de los próximos años

y cada uno de esos detalles que se acuerden tendrán una implicación sobre las haciendas forales y el sistema tributario vasco que deberemos analizar

para adaptar las premisas básicas acordadas a nivel internacional a nuestro propio sistema tributario es pronto todavía para conocer el impacto que ese anuncio pueda tener

en el muy corto plazo debido a la necesidad de ultimar los detalles técnicos de cualquier acuerdo incluso después

para preparar una propuesta de directiva que proponga oficialmente la tasa impositiva corporativa mínima descrita por los países del gmenos siete y ahí en ese ámbito comunitario traducir el soft law

a la obligación legal que exigirá dosis añadidas de negociación y acuerdo ya que

el acuerdo unánime de todos los gobiernos de la unión europea para aprobarse pero no hay que desanimarse hay que ir por este camino y habrá que impulsar habrá que decirle a la unión europea que agilice los procedimientos por lo tanto

las instituciones vascas seguiremos trabajando analizando y evaluando todas estas cuestiones por lo tanto insisto tranquilidad pero activa

trabajando evaluando considerando los planteamientos fiscales que comparten los diferentes organismos internacionales como son

como son la comisión europea el o el fondo monetario internacional

tributario con las adaptaciones como le decía que hagan faltan porque estamos totalmente alineados

tributario a nivel internacional no es aceptable no es aceptable que existan

ahora bien bienvenidos a la reflexión siempre

donde se genere el valor en nuestro caso como es de ley

es en este marco en el que se ha de llevar esta reflexión y estas modificaciones
concierto económico es la llave maestra de nuestro autogobierno eskerrik asko eskerrik asko

gracias señora presidenta buenos días a todos señor consejero buenos días el primero de junio de este año

domínguez director del centro el memorial busca precisamente que los jóvenes que no lo han conocido puedan tener información y conocimiento directo de lo que ha supuesto

nos gustaría que pudieran venir con sus profesores que lo visitaran que lo conocieran y que reflexionaran sobre cómo lo veían ellos antes de tener información y cómo lo ven ahora

no voy a abundar en lo que ya tantas veces se ha discutido aquí no voy a abundar en el dolor de las víctimas ni en lo profundamente injusto que es tener aquí sentadas a personas que amparan

el condenar la violencia que aplauden las llegadas de asesinos al salir de las cárceles los tan llamados ongi etorris son un verdadero problema para la convivencia porque además ensalzan todo aquello que el resto denunciamos como grave y perjudicial el uso de la violencia para conseguir objetivos políticos

unos vencedores guardia civil y estado de derecho que nos brindó la victoria la derrota de eta y un grupo que más terror ha ejercido en toda europa no es casualidad que la violencia de eta sea el protagonista del memorial

les señala directamente y les dice ustedes han perdido ustedes son culpables y es que tienen miedo un miedo natural ante el hecho de que es posible que los ciudadanos

si entienden lo que estos señores hicieron a gente como miguel ángel blanco o como

los descendientes directos de eta su producto su blanqueamiento siguiendo esta línea argumental no entendemos el papel de la otra cara del nacionalismo

evitando a toda costa el desenmascaramiento del partido del señor otegi tan lejos le llevan que incluso eusko alkartasuna con la voz hace una semana desmarcándose

por lo tanto debemos evitar a toda costa que estos señores pasen de rositas que sean vistos como políticos homologables no lo son por eso sentimos verdadero terror cuando leemos el informe la memoria de un país estudios sobre el conocimiento de la historia de eta en españa y en él se ve que el sesenta y tres por ciento de los españoles y el cuarenta por ciento de los jóvenes ya no habla del terrorismo de eta y además siete

que protagonizó además el secuestro más largo perpetrado por eta y solo el treinta y ocho por ciento

cómo podemos evitar esto desde vox tomamos en serio la palabra del señor florencio domínguez debemos convertir el memorial en el eje sobre el que debe pivotar el documento udaberri dos mil veinticuatro plan de convivencia derechos humanos y diversidad

ocho formar sensibilizar y empoderar a la ciudadanía para activar su compromiso con los derechos humanos

es el protagonista de ese documento en el apartado ocho punto dos cuando se habla de formación educación y construcción de una juventud consciente y cito textualmente lo que dice el documento educar dotar de capacidades son precondiciones necesarias para generar dinámicas de transformación social para avanzar no partimos de cero

base construida por un amplio abanico de iniciativas y programas que responde al objetivo se mencionan en ese punto algunos de los programas como el acuerdo gizalegez el programa adi adian que consiste en testimonios directos de víctimas de eta en los colegios a los jóvenes de cuarto de la eso

herenegun o los programas para la prevención de la violencia en los jóvenes

se homologa toda la violencia como si fuese lo mismo hoy no es el día para ello pero después del informe que he comentado acerca del olvido de eta por parte de los jóvenes

sus programas no funcionan debe revisarse la parte de la evaluación porque lo que está claro es que la adquisición de la competencia cívica y social no ha sido tal pasan por el sistema educativo sin saber qué es lo que ha pasado en la historia reciente de españa en la de nuestra tierra y además hablamos de la historia de este siglo

le recuerdo señor bildarratz la suerte de que si haya ubicado en vitoria el citado memorial y es una suerte por la famosa pirámide del conocimiento de egar dale

un diez por ciento de lo que lee un veinte por ciento de lo que ve un treinta por ciento de lo que ve y escucha un cincuenta por ciento de lo que se dice y discute un setenta y cinco por ciento de lo que se hace y un noventa por ciento lo que se dice y hace lo cierto es que hasta ahora nos hemos quedado en la actividad pasiva en eso se han basado mayoritariamente las actividades destinadas a la memoria del terrorismo en el sistema educativo

activa una actividad que se recuerda mucho más y que afecta de un modo directo al alma de los jóvenes al alma del que todo lo visita

los testimonios de los visitantes que han acudido por ello desde vox le pedimos que no se renuncie a este recurso fundamental para nuestra sociedad fundamental para todos nosotros no podemos dejar pasar esta oportunidad y para ello se deben usar todos los recursos a nuestra disposición

no puede quedar un solo estudiante vasco que no pase en algún momento de su formación por el memorial

y debe ser el propio departamento el que haga y organice semejante actuación debe ser el coordinador

los últimos sociómetros han demostrado una cuestión han dejado claro que la ciudadanía vasca no entiende ahora mismo el terrorismo el asunto del terrorismo algo que vemos muy preocupante este es un rigor histórico que adquirirán nuestros jóvenes cuando vean las bombas las armas todos los artefactos que un grupo de personas eta usó para ejercer el terror y practicar el asesinato y la extorsión selectiva seguramente eso podría servir también para que se vea y entienda lo aberrante de los ongietorris la vergüenza de tener aquí sentada a gente que con orgullo dicen ser los herederos de aquello rigor e historias señor bildarratz no hay mejor medicina para mandar a terroristas y afines al lugar que les corresponde al vertedero de la historia

martínez andrea tal y como señaló el lehendakari el día de la inauguración del memorial de víctimas del terrorismo el pasado uno de junio este centro se suma al itinerario general de memoria de euskadi que ya cuenta con

mil novecientos treinta y siete del centro de recursos pedagógicos de derechos humanos eskura

y con el instituto de la memoria la convivencia y los derechos humanos gogora

y la reciente incorporación del espacio martxoak tres memoriagunea

la inauguración de este nuevo centro sobre el que usted pregunta es la culminación del mandato contenido en el artículo cincuenta y siete de la ley veintinueve barra dos mil once de veintidós de septiembre de reconocimiento y protección integral de las víctimas del terrorismo

del terrorismo con sede en euskadi el artículo citado

que el objetivo de dicho centro será y leo literalmente preservar y difundir los valores democráticos y éticos que encarnan las víctimas del terrorismo construir la memoria colectiva de las víctimas y concienciar al conjunto de la población para la defensa de la y de los derechos humanos y contra el terrorismo

nuestro gobierno el departamento de educación viene trabajando más de dos legislaturas en la promoción de la empatía y la solidaridad con las víctimas

de los derechos humanos me gustaría destacar algunos hitos

usted en alguno de ellos ha hecho mención el uno de octubre de dos mil trece la práctica totalidad de los agentes educativos vascos suscribieron en un acto en el palacio kursaal de donostia el acuerdo gizalegez

sobre cuatro bases de educación universal en derechos humanos

primero convivir es aceptar que nuestras perspectivas son siempre incompletas la experiencia educadora de la limitación previene el dogmatismo y promueve el diálogo y la no violencia segundo convivir

entre las dificultades la experiencia educadora del valor positivo previene el fatalismo y promueve el pluralismo

y se ha dado forma a través del programa de bonos elkarrekin una experiencia de colaboración público social para promover iniciativas de formación dinamización y asesoramiento en proyectos de educación en derechos humanos y por la paz la solidaridad con las víctimas

y la resolución pacífica de conflictos el resultado directo de este programa es que desde dos mil catorce se han desarrollado un total de trescientos noventa y cuatro iniciativas en las que han colaborado doscientos noventa y cinco centros educativos y cincuenta y tres entidades sociales acuerdo gizalegez programa elkarrekin no son iniciativas aisladas

ética pero desde el punto de vista educativo también tiene indudable dimensión histórica que debe tener su propio reflejo

a que el alumnado llegue a comprender un periodo especialmente convulso y violento de la historia reciente de euskadi

persigue ofrecer recursos para que el alumnado pueda preguntarse y buscar respuestas sobre cómo y por qué ocurrieron los hechos del pasado y cómo influyen en el presente adicionalmente con una visión integral e integradora nuestro gobierno recientemente ha presentado el plan udaberri dos mil veinticuatro que está ahora

y recepción de aportaciones su finalidad es formar su finalidad es educar y su finalidad es dotar de capacidades todas ellas

dinámicas de transformación social para avanzar hacia el desarrollo humano sostenible partimos de una sólida base construida por un amplio abanico de iniciativas

formación y empoderamiento para la transformación social desde nuestro gobierno desde el departamento de educación también se lleva trabajando desde hace tiempo sobre los aprendizajes de dignidad humana

mediante una experiencia de escucha de testimonios de víctimas a través del módulo educativo adi adian el tratamiento que debe darse

la injusticia de la violencia la solidaridad con las víctimas

en el sistema educativo vasco desde hace años el programa adi adian y el resto de proyectos educativos desarrollados en colaboración con la viceconsejería de derechos humanos convivencia y cooperación han posibilitado que más de

hayan escuchado en directo los testimonios de víctimas y hayan visitado exposiciones que abordan de manera crítica la violencia y el terrorismo que hemos padecido

en euskadi esta experiencia nos ha demostrado que la escucha activa de los testimonios de las víctimas tiene un alto valor pedagógico hemos visto que escuchar a las víctimas a las personas que han sufrido la sinrazón del terrorismo empatizar con ellas ponernos en su lugar contribuye de manera determinante a reforzar la cultura de los derechos humanos el compromiso con el nunca más

y en respuesta a su pregunta es nuestro objetivo seguir promoviendo la escucha de los testimonios de víctimas por parte del alumnado de secundaria bachillerato y universidad en colaboración con la viceconsejería de derechos humanos memoria y cooperación lo seguiremos haciendo a través de iniciativas que desde distintos ámbitos

y los alumnos señora martínez me preguntaba sobre cómo vamos a tratar en el departamento de educación esta cuestión a la que usted
hace referencia y le respondo con mucho cuidado y mucho respeto eskerrik asko eskerrik asko

en palabras de raúl lópez romo el responsable del área de educación y exposición del centro se busca homenajear a las víctimas defender los valores democráticos del estado de derecho informar sobre décadas de terrorismo y conmover para que el público salga sabiendo más empatía y añadía por eso está ubicado en el país vasco es aquí donde sigue existiendo una parte de población radicalizada que ve con buenos ojos atentados del pasado y es donde más cabe intervenir cualquier rastro de justificación entenderá que no se trata solo de una cuestión de vox

el señor raúl lópez romo nosotros creemos que debemos erradicar esa ideología luchando con todo y aunque la educación es el camino evidentemente más lento es el que más tarda en dar sus frutos creemos que es el más estable de todos ellos por ello abundamos e insistimos en la necesidad de que ustedes desde el gobierno

a nuestra región usted ha hablado de muchos planes de este gobierno a los que yo ya he hecho referencia en mi primera intervención porque los he revisado todos ellos

lo que hemos sufrido es una violencia que ha hecho que más de doscientos mil personas hayan tenido que abandonar su tierra que generó más de ochocientos

quiero abundar en la pirámide del conocimiento que antes le he comentado hasta el momento hemos trabajado por la vía de las actividades pasivas para trabajar el asunto del terrorismo

los estudiantes en su gran mayoría no incorporan la información la presencia del memorial busca abundar en la parte activa

les puedo asegurar que esa experiencia es de las que se quedan para siempre de las que no se olvidan

si por el contrario lo que queremos es abundar en la memoria recuperar nuestro pasado y fomentar de verdad el pensamiento crítico entonces es necesario tanto como el comer acudir a este lugar organizar todo para que los jóvenes vascos que están matriculados en alguno de los niveles obligatorios deban pasar por allí escuchar los testimonios y tomar conciencia de lo que hace no tanto tiempo eran nuestras calles

pues muchos de ellos ven cómo en nuestra autonomía tenemos que ir con precaución incluso algunos se niegan a coger banderas de españa por las consecuencias que el hecho pueda tener

ven que la realidad es otra muy diferente que puedes llevar la bandera de españa con toda naturalidad

algo está pasando nuestra sociedad está enferma señor bildarratz en este sentido gravemente enferma por culpa del ultranacionalismo

no hay normalidad democrática no tenemos las mismas herramientas unos partidos y otros para aquellos que defienden romper españa hay plena libertad para aquellos que la defendemos la condena al ostracismo

vivamos en una región más justa y más solidaria

visitar el memorial y eso es lo único que le pedimos señor

de educación que lo incorpore dentro de sus planes de educación muchas gracias

tal y como le he indicado en mi anterior intervención nuestro objetivo es seguir promoviendo la escucha de los testimonios de víctimas por parte del alumnado de secundaria formación profesional bachillerato y universidad en colaboración con el departamento de igualdad justicia y políticas sociales y por qué y por qué porque es responsabilidad de este departamento promover encauzar iniciativas programas y materiales diversos para ponerlos a disposición de los centros educativos quienes en última instancia

de los mismos y su adecuación al marco curricular en general

en particular así en todos los ámbitos y disciplinas y muy especialmente en ámbitos como el que nos ocupa es decir los relacionados con la deslegitimación radical

la dignificación de las víctimas y la consolidación de la cultura de los derechos humanos señora martínez como ya le he indicado anteriormente

de las víctimas del terrorismo este centro se configura bajo la figura de una fundación del sector público estatal y su órgano de gobierno

este gobierno corresponde por tanto articular a través de este órgano las actividades e iniciativas que partan del mismo con un carácter

andadura que lleva euskadi en la deslegitimación del terrorismo me gustaría poner en valor en este punto el trabajo desarrollado por el consejo vasco de participación

desde su creación en dos mil ocho la ley cuatro barra dos mil ocho de reconocimiento y reparación a las víctimas del terrorismo de euskadi creó dicho consejo con la finalidad de canalizar la participación de las víctimas del terrorismo en todas

y proponer a las administraciones públicas la puesta en marcha de políticas concretas

un consejo en el que está representada ampliamente tanto la sociedad civil a través de las diferentes asociaciones de víctimas del terrorismo fundaciones

el departamento de educación un consejo que recientemente el pasado mes de marzo ha hecho entrega a nuestro lehendakari de un documento aprobado por unanimidad por unanimidad sobre los pasos a dar en materia de reconocimiento y de reparación como le digo un documento consensuado entre diferentes asociaciones de víctimas y las instituciones vascas que propone medidas concretas a desarrollar en materia de reconocimiento y reparación de las víctimas del terrorismo así como para mejorar y hacer más eficiente la contribución de estas víctimas tanto en el plano educativo

crítica sobre el pasado y en general en el diálogo entre diferentes un documento que es el fruto de tres años de trabajo en el seno del propio consejo y recoge un punto específico el punto dos concretamente de la aportación

todas las iniciativas que seamos capaces de desarrollar en el ámbito de la deslegitimación del terrorismo suman en euskadi tenemos

y los esfuerzos de todos los agentes e instituciones nunca han sido nunca son ni nunca serán suficientes eskerrik asko

había soñado que atravesaba un bosque de higueros donde caía una llovizna tierna y por un instante fue feliz en el sueño pero al despertar se sintió por completo salpicado

gracias señora presidenta señor fernandez de betoño

usted bien ha dicho el pasado martes aprobamos en el consejo de gobierno el decreto de vivienda deshabitada y de medidas de cumplimiento de la función social de la vivienda

en la presentación del decreto comenté que el derecho de la ciudadanía a disfrutar de una vivienda obliga a las administraciones las condiciones necesarias y el establecimiento de normas pertinentes para hacer efectivo ese derecho en euskadi comenzamos a andar ese camino en junio de dos mil quince con la aprobación de la ley de vivienda una ley pionera que

entre los que se encuentra la movilización de la vivienda deshabitada la ley regula la figura

por el departamento competente en materia de vivienda del gobierno vasco

la audiencia a los titulares de la vivienda es por tanto la propia ley de vivienda la que en su artículo cincuenta y seis punto tres otorga a los ayuntamientos la potestad de la declaración de una vivienda como deshabitada en primera instancia

previa audiencia al ayuntamiento respectivo tal y como se recoge en el artículo

de este decreto como le decía el decreto de vivienda deshabitada que acabamos de aprobar sigue fielmente el espíritu y la letra que marca la ley de vivienda regula

y posibilita la adopción de las actuaciones previstas en la ley tendentes a conseguir que las viviendas cumplan su finalidad social y se destinen al uso habitacional

como otras destinadas a penalizar el mantenimiento de viviendas desocupadas de forma injustificada con el pago de un canon anual e incluso

y en áreas de acreditada demanda y necesidad de vivienda el camino para llegar aquí no ha estado exento de dificultades

entre la aprobación de la ley de vivienda en junio de dos mil quince y la aprobación de este decreto pero no hay que olvidar que varios capítulos de la ley fueron recurridos por el gobierno de mariano rajoy entre ellos precisamente el referido a la vivienda deshabitada y las fórmulas

durante varios años las medidas previstas en la ley en este asunto estuvieron suspendidas de manera cautelar por el tribunal constitucional mientras se instruía su pronunciamiento la sentencia

de las cuestiones también en este asunto se produjo a finales de septiembre de dos mil dieciocho esto permitió desbloquear la propia ley en asuntos de enorme trascendencia

los trabajos de elaboración del decreto en los términos establecidos en la propia ley han sido dos años y medio de trabajo intenso de diálogo y de búsqueda de consensos con los agentes implicados para tratar de sacar adelante el mejor decreto posible

es movilizar la vivienda vacía usted me interpela sobre qué vamos a hacer

los ayuntamientos de la comunidad autónoma lleven a cabo el proceso de declaración de vivienda vacía el decreto al igual que la ley

y tiene todo el sentido que sea así porque el ayuntamiento es el principal conocedor de la realidad municipal

como de la problemática existente en cuanto al número y características de la vivienda deshabitada en su municipio resulta lógico por tanto que sea el ayuntamiento en primera instancia quien adopte la decisión de establecer el procedimiento de declaración de vivienda deshabitada

por otra parte hay que tener en cuenta que la problemática de la vivienda deshabitada no tiene por qué tener el mismo tratamiento en todos los municipios nuestro interés y entendemos

sobre todo en las áreas en las que existe una demanda real de vivienda porque la demanda de alquiler en euskadi se concentra en los ámbitos urbanos de una manera muy destacada y en ciertos colectivos sociales como personas jóvenes y colectivos con niveles de ingresos medios y bajos

de la compra resulta inaccesible y más aún el de la vivienda libre

el cuarenta por ciento de la demanda general de vivienda se agrupa en torno a las tres capitales vascas y en un veintiocho por ciento de los casos en los municipios vascos comprendidos entre veinte mil y cien mil habitantes

esta concentración urbana se agudiza todavía más de las

el cuarenta y seis por ciento lo hace en las tres capitales vascas mientras que un treinta por ciento requiere una vivienda en los municipios entre veinte mil y cien mil habitantes esto quiere decir que una gran parte de la demanda de vivienda

se concentra tan solo en una veintena exactamente diecinueve de los doscientos cincuenta municipios existentes en euskadi

los datos evidencian por una parte que la necesidad de vivienda no es homogénea en todas las localidades de euskadi y por otra que existen zonas menos

y una escasa o nula demanda de vivienda y por lo tanto no sería necesario intervenir de urgencia

hay que establecer prioridades y centrarse inicialmente en los ámbitos urbanos más tensionados para poder actuar después de manera progresiva y coordinada sobre otros ámbitos en resumen contestando directamente a su interpelación es en primera instancia a los ayuntamientos

en el decreto evidentemente por parte del gobierno tenemos confianza en que esto va a ser así sobre todo en los municipios donde hay tensión

y esto es algo que además está siendo esperado por los municipios para poder intervenir el problema

sobre las dudas que puedan tener los ayuntamientos en desarrollar esto efectivamente yo creo que está recientemente aprobado

existe tensionamiento va a haber interés municipal

el gobierno vasco directamente si es que así es necesario y en el caso de que lo fuera lo haríamos pero la opción colaborando directamente con los municipios para que esto se pueda desarrollar en base a esa colaboración interinstitucional que es fundamental para que un decreto de esas características

tanto su escasez como sus precios preocupa a todas las instituciones y preocupa también a los ayuntamientos sobre todo aquellos que tienen una fuerte demanda de vivienda

y dar así una respuesta a las necesidades de vivienda de los vecinos y vecinas

como decía en todo caso el decreto también otorga al gobierno esa posibilidad esa labor subsidiaria de manera que podamos desde el ejecutivo

y cuando las circunstancias de demanda y necesidad de vivienda resulten acreditadas

y en cuanto a los números a los cálculos que

son estimaciones evidentemente son estimaciones basadas en lo que es la observación de la realidad y en la medida de que pasamos de lo que son las propias estimaciones teóricas a poner en marcha en la práctica un decreto de las características pues veremos cuál es la realidad de lo que es la situación de las viviendas deshabitadas el número estimado de quince mil ciento treinta y cuatro me parece de viviendas deshabitadas que se podrían declarar

son viviendas vacías que llevan más de dos años deshabitadas y que no existe una

para que estén así pero bueno la práctica nos va a dar realmente cuál es la imagen real de la situación

aún no ha echado a andar el decreto habrá tiempo de hacer balance todo llegará

ahora bien me gustaría dejar una cosa clara el objetivo de esta norma es la movilización

y la mayor virtud de este decreto es que pone el foco en la función social de vivienda y establece medidas para poder cumplirla pero también le digo que ni tiene vocación recaudatoria ni afán estas medidas son instrumentales para conseguir su propósito

y en este sentido ponemos a disposición de la ciudadanía

que garantiza el cobro de la renta mensual del alquiler o al programa de intermediación asap

al mismo tiempo que esta cumple su función social ha costado mucho esfuerzo conformar una norma de esas características porque

pero también ponderada es pionera pero también garantista y creo no equivocarme

una norma parecida se han desarrollado experiencias en forma de impuestos

dirigidas a propiedades de grandes tenedores y entidades financieras el decreto de euskadi

que nos afecta a todos es además una medida que no trata de imponer sino que proporciona a las administraciones locales

para que las viviendas vacías de sus municipios cumplan con la función social que tienen encomendada por la ley el proceso de tramitación

a muchos colectivos y ha contado también con la participación de los ayuntamientos a través de eudel que ha visto incorporadas parte de sus alegaciones y sugerencias y el texto

de gobiernos locales también se ha acordado con eudel la organización en septiembre

sobre este decreto a partir de ahí estamos a disposición de todos los ayuntamientos grandes y pequeños para ayudar

proporcionar equipos de apoyo y asistencia en términos similares

de otros programas de manera que cualquier ayuntamiento vasco que así lo decida tendrá nuestro apoyo efectivo

de vivienda vacía aunque como ya he dicho en última instancia

allí donde exista necesidad y no lo haya hecho el ayuntamiento

actuaremos por otra parte no existe una uniformidad en la problemática de vivienda en los distintos

hay situaciones diversas intensidades variables e incluso

fenómenos distintos de tensionamiento luego la respuesta de la administración no puede ser café para todos

como ya le he dicho nuestro interés y entendemos que el de los propios municipios

de hecho algunos ayuntamientos como el de bilbao ya nos ha hecho llegar por boca de su concejal de vivienda su disposición para empezar a desarrollar el decreto y esperamos que el resto de grandes ciudades sigan su ejemplo

aquellos municipios en los que existe necesidad de vivienda y un desequilibrio entre la oferta y la demanda van a tener interés

y aquí estaremos para acompañarlos en el camino muchas gracias eskerrik asko arriola jauna

bien señor arriola preguntamos hace unas semanas sobre el retraso

y desde entonces las malas noticias no han dejado de faltar y las controversias públicas también el soterramiento

en el aire ahora en vitoria y según lo dicho por el gobierno de españa

echó recientemente y que ha suscitado una discrepancia una polémica pública política

partidos responsables en relación con la realización del soterramiento ferroviario en la capital de euskadi coincidiendo con la llegada del tav es decir coincidiendo con la llegada del tren de alta velocidad como estaba establecido

asuma estoicamente que el soterramiento no se lleve a cabo esta es la cuestión y por eso le preguntamos cuál es la posición política del gobierno vasco en relación con el definitivo soterramiento ferroviario de vitoria gasteiz coincidiendo con las obras del tren de alta velocidad

gracias señora presidenta señor carmelo barrio

y yo como consejero de planificación territorial vivienda y transportes siempre hemos mostrado nuestro total compromiso con la integración soterrada del tren de alta velocidad en vitoria gasteiz de hecho la integración soterrada en la capital alavesa es una apuesta del conjunto de las instituciones implicadas en el desarrollo de esta infraestructura

y gobierno de españa eskerrik asko arriola jauna barrio jauna zurea da hitza sí
muchas gracias señora presidenta señor arriola algo está fallando

cambios estos retrasos los incumplimientos de plazos la falta de trabajo en relación con los proyectos del tren de alta velocidad en euskadi están enturbiando

son los compromisos en relación con lo que tiene que ser esta importante infraestructura nosotros le

a que no retrase el soterramiento a que lo lleve a cabo con la llegada del tren de alta velocidad

existe una especie de resignación en su actitud con el tema de la alta velocidad a su llegada a euskadi y también una no sé parece una clara sensación de rendirse a las imposiciones

todo esto estaba planificado y ya se había convertido

de todas las instituciones comprometidas la que representa usted el ayuntamiento de vitoria la diputación de álava

instalado este proyecto en el futuro de vitoria en su desarrollo como ciudad es una oportunidad única que no puede pasar a la resignación

regenerador modernizador de esta ciudad está claro que las declaraciones del delegado del gobierno poniendo en duda la financiación del proyecto

usted hablaba también hace unas semanas de retraso

la falta de concreción yo creo que es hora de actuar de poner la seriedad y la firmeza sobre la mesa son necesarias actuaciones señor arriola

su gobierno y su departamento con otras instituciones con el ayuntamiento con la diputación

al gobierno de españa a cumplir las obligaciones contraídas con la ciudad en relación con la alta velocidad

un compromiso económico para garantizar y acelerar los trabajos de ejecución pendientes resolviendo

paralizadas desde dos mil diecinueve y desde luego a instar a que la conexión de la y vasca con pamplona y el corredor del mediterráneo se realice

se necesita señor arriola una mayor convicción un nuevo compromiso con el tav y no esta situación desesperante muchas gracias

y desde el mismo momento en que asumí la responsabilidad en el área de transportes he puesto de manifiesto mi compromiso con la internación soterrada del tren de alta velocidad

un compromiso que como ya le he comentado es compartido con el resto de instituciones implicadas en esta infraestructura tanto por las administraciones locales como por el ministerio de transportes con este objetivo se creó en su día la sociedad alta velocidad vitoria gasteizko abiadura handia de la que todos formamos parte

una sociedad que en su última reunión celebrada el día diez de mayo y en el que estuvimos presentes el alcalde de vitoria gasteiz el diputado general de álava

decidimos compatibilizar la redacción del proyecto constructivo del soterramiento de vitoria

y la tramitación ambiental que está llevando a cabo el ministerio y hacerlo sin esperar a que este último

de intentar acortar plazos y en ello estamos trabajando este mismo martes la comisión técnica de la sociedad ha acordado sacar a licitación

así que señor barrio en ese tema no hay controversia ni polémica la apuesta por parte del departamento es clara

como también y en condición de consejero de transportes tengo una apuesta clarísima

en que sea posible y en este sentido comentar que el ministerio ha anunciado que el estudio informativo del tren de alta velocidad entre burgos y vitoria se va a aprobar de forma inminente una noticia

un horizonte más que razonable para la finalización de las obras de este tramo si esto fuera así y tenemos el tav en júndiz en esas fechas a las puertas de vitoria gasteiz no cree usted que tendría sentido

si no están acabadas no sería razonable articular una solución para que la ciudadanía no tuviera que esperar más y pudiera viajar

creo sinceramente que esa es una posibilidad que no hay que menospreciar

no supone ni renunciar a la integración soterrada del ferrocarril en vitoria gasteiz ni ponerla en cuestión porque la apuesta que hemos hecho y que vamos a seguir manteniendo como gobierno de la mano del resto de administraciones vascas concernidas y del ministerio de transportes

o interpelamos mejor dicho a la consejera de salud en relación a la situación de los menores de edad mayores de doce años

y en situación de gran vulnerabilidad por motivos de salud

de salud y en concreto las últimas semanas también sobre la situación de los

no institucionalizados y grado tercero bueno todos conocemos que

diferentes versiones de la estrategia de vacunación llevamos la séptima si no recuerdo mal la última fue aprobada el once de mayo el pasado once de mayo

en la primera estrategia de vacunación la primera que se aprobó ya digo que llevamos siete se señalaban como grupos prioritarios los siguientes el primero

que están en centros residenciales el segundo nivel eran los sanitarios de primer nivel y el tercero en el tercer grupo los grandes dependientes no institucionalizados grado tercero

en los centros ocupacionales son personas que necesitan ayuda para realizar las actividades más cotidianas de su vida diaria como comer vestirse o incluso moverse y dentro del cuarto grupo estaban los mayores de

años tenemos que decir claramente que el gobierno vasco incumplió esta estrategia de vacunación primero vimos un claro retraso en su

de los sanitarios y se saltaban los grupos

el anterior y concretamente se saltó el

no institucionalizados por lo tanto tenemos que recordar como decía nuevamente que la estrategia de vacunación en estos primeros momentos fue muy desordenada

a los mayores de ochenta noventa años por no recordar el episodio de los mayores de cien años que

radar de osakidetza saltándose como digo a los

yo me voy a referir un poco a la situación de los menores

porque creo que es una cuestión que no ha sido abordada con la diligencia y con la atención que merecía este colectivo priorizándolos a la hora de su vacunación la situación de estos menores es la siguiente son menores con parálisis cerebral con problemas para tragar no pueden llevar mascarillas

mayor del setenta por ciento tienen problemas conductuales de comportamiento babeo tienen problemas para guardar la cuarentena

todo lo tocan y todo el rato también se llevan las manos a la cara y necesitan ayuda para realizar todas las actividades de su vida diaria

ir al baño vestirse y muchísimas más cosas yo le pido a este gobierno y a la consejera en particular que les mire por un segundo a estos niños

la situación de estos niños y de estas familias es absolutamente desesperante por la inacción de este gobierno en relación a este colectivo que está en una situación como digo de gran vulnerabilidad son niños absolutamente son los menores no institucionalizados mayores de doce años que están en sus casas y que necesitan de un cuidador de sus padres o una persona cuidadora constantemente

y es un tema que lo he seguido señora consejera y en ese sentido tengo que decirle que tengo información exhaustiva sobre cómo se está procediendo a la vacunación de estos menores a estos menores se les está vacunando estoy hablando de menores mayores de doce años

porque están llamando están llamando insistentemente a osakidetza a su centro de salud se están quejando y ante tal desesperación algunos están vacunados pero esta es la excepción

en relación a la vacunación de este colectivo como decía el pasado once de mayo se aprobó la última estrategia de vacunación y se señala en el punto seis que una vez que se produzca la correspondiente autorización de la vacunación de los menores entre doce y quince años se propone la vacunación

de muy alto riesgo o las personas a partir de los doce años en situación de gran dependencia y aquellas en centros de personas con discapacidad intelectual centros tutelados y centros de educación especial

porque insistían por la presión ya tenemos un criterio claro

nacional de salud como digo en relación a este colectivo que dice que cuando se autorice la vacunación se proceda a su vacunación pues ya se procedió

y hay que decir que sigue sin haber un criterio por parte del gobierno vasco

esta semana o a raíz de esta interpelación yo las últimas noticias que tengo

se les siguen vacunando por la presión que están ejerciendo por la desesperación de sus padres por la insistencia de las llamadas hoy mismo me han comunicado otro caso esta mañana menores que van en los mismos autobuses en esta situación que unos sí están vacunados y otros no están vacunados por eso señora consejera

salvo ya le digo que haya modificado en las últimas horas porque yo tengo conocimiento y esta información creo que tiene la oportunidad en este parlamento

y no seguir defraudando a miles de familias y a las asociaciones que están detrás de estas familias hablamos de asociaciones de autismo de parálisis

de discapacidad intelectual yo creo que ya este gobierno se tiene que hacer cargo de esta situación

niños absolutamente vulnerables que tienen dificultades de comportamiento

conductuales que necesitan todo tipo de ayuda para hacer las actividades diarias que son un vector de contagio entre sus propios familiares entre los niños con los que están

por lo tanto señora consejera yo creo como le digo que sería una buena noticia

de verdad que usted hoy anunciara alguna noticia al respecto besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko garrido andrea sagardui andrea zurea da hitza

personas con gran discapacidad y personas en situación de vulnerabilidad por motivos de salud

pueden sonar parecidos pero que no son lo mismo y toda la documentación técnica que se ha generado

utilizando uno u otro término porque el riesgo ante la covid no es el mismo en consecuencia

sino de dependencia que no es lo mismo una persona puede tener una gran discapacidad pero no una gran dependencia porque el entorno social el físico

de la misma forma tener una enfermedad grave no supone necesariamente tener una mayor vulnerabilidad

de la enfermedad por eso la estrategia de vacunación contra la covid documento cuya lectura recomiendo y que está elaborado por personal técnico

universidades asociaciones científicas y colegios profesionales entre otros define muy bien quiénes son las personas vulnerables dice qué vacuna hay que administrarles y cuándo en función de la priorización de unos colectivos u

casi al unísono consejo interterritorial del sistema nacional de salud estrategia de vacunación frente a la covid diecinueve en españa

once de mayo sí efectivamente séptima actualización las páginas quince y dieciséis

con necesidades de intensas medidas de apoyo que no estén actualmente institucionalizadas

según la ley de dependencia de la ley treinta y nueve barra dos mil seis de catorce de diciembre aquellas que hayan solicitado el reconocimiento y las que aun no habiendo

medicamente acreditado por tener enfermedades que requieran intensas medidas de apoyo para desarrollar su vida

aquellas institucionalizadas y también las no institucionalizadas

se podrían vacunar en la misma visita que las personas a las que asisten si no se han vacunado con anterioridad estas personas dependientes y cuidadores profesionales se vacunarán con vacunas de arn mensajero

en función de la edad de la persona y de la disponibilidad en estos momentos puesto que se ha acordado el uso de la vacuna de jansen

se priorizará a las personas grandes dependientes de difícil accesibilidad

de base y explica la condición de gran dependencia grado tres

y por su pérdida total de autonomía física mental intelectual o sensorial

indispensable y continuo de otra persona o tiene necesidades de apoyo generalizado para su autonomía personal no hay discriminación

y dieciséis se aborda la cuestión de la mayor vulnerabilidad derivada de enfermedad

las personas con condiciones de muy alto riesgo a partir de dieciséis dieciocho años se comenzarán a vacunar de forma paralela a las personas del grupo cinco b personas entre setenta y setenta y nueve años de edad si no les corresponde antes por grupo de edad las condiciones que se han considerado para priorización son

trasplante de órgano sólido y lista de espera para trasplante de órgano sólido

hemodiálisis y diálisis peritoneal enfermedad oncohematológica cáncer de órgano sólido en tratamiento con quimioterapia citotóxica

inmunodeficiencias primarias infección con el vih con menos de doscientos células por millón

antirretroviral eficaz y carga viral indetectable

con cuarenta y más años de edad fibrosis quística

se ha vacunado a todas las personas institucionalizadas y no institucionalizadas con dependencia grado tres o que cumplan estos criterios de vulnerabilidad

se está vacunando a partir de dieciséis años y también a todos y a todas sus cuidadores los menores de dieciséis aun aun no

su vacunación tenemos la indicación de un primer estudio de cuál es la vacuna que sí ha superado la certificación para aplicar a ese colectivo no tenga ninguna duda

establezca la vacunación a las personas de entre doce dieciséis años aquellas personas que teniendo

o cumpliendo alguno de los requisitos de enfermedades especialmente vulnerables

como lo han sido repito las anteriores eskerrik asko eskerrik asko sagardui andrea

entonces la decisión de vacunar a los menores de doce entre quince años

arbitraria porque conozco conozco le podría pasar los nombres y apellidos

y están llamando porque me consta se les está vacunando porque están llamando porque están llamando esa es la excepción o sea usted me dice que no está autorizada cosa que ahora le voy a decir que no es así

en el punto seis se dice claramente vacunación de adolescentes y preadolescentes

para su autorización en el grupo de edad doce y quince años una vez autorizada la indicación

y se detalla expresamente página diez personas a partir de doce años de edad con condiciones de muy alto riesgo y personas a partir de doce años de edad

estas personas se podía empezar a vacunar una vez

y la ema lo ha autorizado la ema lo autorizó la semana pasada señora consejera

de este colectivo por eso en otras comunidades autónomas se está vacunando por eso ustedes aquí de forma arbitraria están vacunando porque tienen la cobertura para hacerlo

no tienen un plan no tienen un criterio claro general de vacunación a este colectivo de los menores dependientes no

son niños le vuelvo a repetir son niños que no llevan mascarilla que tienen problemas conductuales que babean

que son vectores de contagio muy importantes y esos niños en euskadi

las excepciones que se han vacunado han sido a base de llamada y a base de mostrar su

no puede ser que un gobierno me diga a mí que es que esos niños no están siendo vacunados porque no

cuando conozco casos con nombre y apellido que unos sí están vacunándose

porque están presionando y los que no están presionando debidamente parece ser

que se rectifica esta dramática situación póngase en la situación de estas familias no son pocas familias y aunque fuesen pocas familias

de estas familias de estos niños de estas asociaciones su piel señora consejera póngase en su piel míreles a la cara

están siguiendo este pleno están siendo muchos de ellos este pleno dígales que no les vacuna porque no puede o dígales que

de una forma no adecuada y que van a rectificar esa estrategia ese plan de vacunación en relación a este colectivo pero dígales algo porque le están esperando le están escuchando dígales por favor cuando salga a esta tribuna alguna respuesta porque yo creo que se la merecen yo creo que no es de recibo

esté continuamente en el interrogante

a unos no yo creo que no es de recibo y no es de un gobierno serio

esta actitud y no tener un criterio como digo generalizado en relación a un colectivo que este gobierno tendría que haber tenido un criterio hace tiempo en relación a este colectivo no se puede andar así a salto de mata

a otros no este porque ha llamado cinco veces el otro como ha llamado dos todavía no lo vacuno no señora consejera por favor diga aquí algo y dé una solución
que le digo que le están esperando a estas personas eskerrik asko garrido andrea sagardui andrea zurea da hitza

continuamente de forma continua siempre porque parece que lo que le digo en pleno o le digo en comisión luego usted siempre intenta

hacia lo mismo los criterios de vacunación son los que son usted dice que yo leo lo que quiero y usted dice lo que quiere porque usted dice

las vacunas para su autorización se han aprobado

es la que de momento ha conseguido dar el primer paso para que se vaya implementando eso dígalo también

que nosotros cumplimos con lo establecido en la estrategia de vacunación

en el tema de la gran dependencia especialmente y no me diga que no tenemos plan porque usted sabe muy bien que tenemos plan

esa vacunación prioritariamente que todos los institucionalizados

fueron vacunados junto con las personas mayores

y que seguidamente además todos y todas las cuidadoras de aquellas personas

fue parte de nuestra estrategia como debe ser no les hacemos ningún favor hacemos justicia y a todas se les vacunó prioritariamente

entre doce y dieciséis años con gran dependencia

o con enfermedades especialmente vulnerables que son las que ya conocemos porque están ahí en el listado y lo tasa claramente

en el momento en el que se establezca la vacunación

ellos serán prioritarios por supuesto que van a ser prioritarios y lo que antepone la estrategia

estos niños tienen que ser considerados prioritarios y nosotros lo vamos a hacer

perfectamente ordenada identificada

si algo tiene este país es la suerte no solo de tener un sistema de salud consolidado sino un sistema

que trabaja transversalmente y que atiende todas las necesidades de esos colectivos especialmente vulnerables señora garrido y ese es el mensaje que tienen las familias y ese es el mensaje que saben las familias que se va a cumplir porque siempre los tenemos nosotros presentes

excepcional que se haya vacunado tendrá usted algún caso excepcional igual habría que revisar cuáles son las condiciones de ese no no me haga señas ni teléfono ni de un montón usted sabe bien que no usted sabe bien

ha sido la vacunación de los colectivos con mayor riesgo entre los que estaban las personas con un grado de dependencia se lo he dicho antes con independencia de la edad para nuestros siempre prioritarios pero también con todas las garantías sanitarias requeridas al respecto no se preocupen esas familias porque sus hijos sus hijas la misma manera que les hemos priorizado a los cuidadores principales de todas ellas

en el calendario de vacunación serán también vacunadas eskerrik asko eskerrik asko

porque es sabido que los espacios cerrados son espacios de riesgo es sabido por todos y por todas

los medidores de ce o dos las ayudas para la mejora de la aireación o el uso de los test rápidos para hacer a la ciudadanía

badugu hor ezartzen dena su gobierno ha iniciado los trámites para la aprobación de una nueva ley de cooperación supuestamente basándose en que se tiene que actualizar que se tiene que contextualizar en base a nuevos retos en base también por ejemplo a nuevos paradigmas que

treinta desde nuestro punto de vista no es ni urgente ni necesaria la reforma de una ley

de cumplir no tiene tanto tiempo y además pensamos que hay otros instrumentos para adaptar la nueva realidad que en principios generales podemos coincidir a los instrumentos de la cooperación podía ser el plan director podían ser las orientaciones generales que se aprueban

mayoritario ni minoritario prácticamente la ley de cooperación vigente ni hay una demanda social para cambiarla

hay que recordar que la ley que tenemos ahora mismo en vigor la ley del año dos mil siete fue fruto de un gran consenso político

empujado por una gran participación social y liderado desde el espacio de la fuerza política que en estos momentos represento en esta cámara

la ley de la carta de justicia y solidaridad con los países empobrecidos que también se aprobó y que está en vigor en nuestra legislación lege horretan

den todo esto como decía nació de una fuerte demanda social de un compromiso histórico

vasco pero además no hay que olvidar que el sector de la cooperación

los agentes que actúan en la cooperación que hay más de cuarenta mil personas que son socias de distintas

donantes hay cerca de cuatro mil personas voluntarias en el sector de la

el setenta por ciento de ellas son mujeres que hay más de trescientos personas que profesionalmente se dedican al sector de la cooperación y

había más de setecientos proyectos activos en las distintas áreas de la cooperación

y cerca del siete por ciento para acción humanitaria las cifras que no son absolutas pero

que podemos tener son más de setenta millónes de euros destinados a la cooperación en euskadi en el año dos mil diecinueve y eso se traduce en un setenta y cinco por ciento de fondos públicos

esto era el contexto de la importancia que tenemos en euskadi a la cooperación y desde nuestra formación política pensamos que

social tiene que tener un papel destacado para lo público y también un papel prioritario para los agentes de la cooperación y prioritariamente dentro de esos agentes

eso se plasma en la legislación actual que tenemos en vigor y en los distintos planes de la agencia vasca de cooperación y desde nuestra humilde opinión

en el nuevo proyecto de ley pero además además de esas dos vertientes la cooperación

y también las externas las relaciones que tenemos con otros con otros estados y con otras realidades sabemos eso lo hemos dicho no es el objeto completo de esta interpelación que la coherencia tiene que ser también con el propio modelo de desarrollo y en estos momentos el modelo de desarrollo vigente no solo en euskadi pero en concreto en euskadi

para sostenerlo eso nos indica el tamaño

del reto que tenemos de transformación del modelo económico y social y de consumo y también que cada año el día en el que se acaba la biocapacidad del planeta cada día es más pronto por eso es importante que si hacemos bien la política de cooperación en coherencia

públicas tampoco es coherente ser ejemplares

es pequeño pero importante en la resolución de conflictos en los procesos

directamente y sobre todo a través de convenios y de financiación de distintas iniciativas participa no es coherente

la otra ley del año dos mil diecisiete de la carta de solidaridad de países empobrecidos en la que se prohíbe la financiación

en euskadi y que desde nuestra fuerza política estamos trabajando intensamente tanto aquí como en otros ámbitos para que esa realidad cambie cuanto antes

de políticas donde se va a colocar también el órgano encargado

transversalizar la coherencia de políticas cómo transversalizar

no es suficiente con que se haga una buena política de cooperación si el resto de las políticas siguen inercias del pasado y lo mismo

dos mil treinta que tiene mucho que ver con la coherencia de políticas y en cuanto al presupuesto esto es el tema siempre

que se tiene que destinar el cero coma siete por ciento del presupuesto

lo que marca como objetivo real es el cero coma siete por ciento del presupuesto consolidado del gobierno vasco en el año dos mil doce eso evidentemente estamos en el año dos mil veintiuno no se ha cumplido

por resumir señora artolazabal desde elkarrekin podemos izquierda unida vamos a participar en ese debate de ese proyecto de ley

con una petición muy clara de que se trabaje con un consenso político y social no nos podemos permitir romper los consensos que hay en esta materia en euskadi lo hacemos con el convencimiento de que actualizar sí pero que no puede renunciar a un objetivo primordial

y la aspiración a transformarlo lo haremos también desde el fortalecimiento

de políticas y a la agenda dos mil treinta lo haremos si se produce un fortalecimiento

lo haremos también si se produce desde un fortalecimiento del trabajo en común con las organizaciones del sur que son las que conocen

que acompañan las que conocen el contexto y los que garantizan

lo haremos también si se decide en un pacto amplio de país cuál será la forma también de transversalizar la coherencia

y a no renunciar como decía al objetivo principal que tiene esa agenda que es transformar el

vigente y por supuesto por último pero no menos importante la educación para la transformación social tiene que pasar de ser

política pública de cooperación a ser una acción transversal también con un papel destacado del departamento de educación que no pueden ser compartimentos

y le agradezco la intención que ha demostrado en su intervención a la hora de compartir y aportar las mejoras que desde su grupo y desde su formación van a realizar para alcanzar una ley de cooperación que incluya todos esos objetivos que bueno que en su inmensa mayoría podemos compartir en el año dos mil siete como usted decía se aprobó la ley

esta ley fue objeto de unos profundos debates y dio amparo legal a más de veinte años de solidaridad y de cooperación vasca a favor de la justicia y del desarrollo de los pueblos empobrecidos los desafíos que enfrenta la cooperación vasca en dos mil veintiuno son sin embargo significativamente diferentes a los de dos mil siete han pasado catorce años ya señor martínez desde la aprobación de aquella ley y el mundo también

las herramientas para poder abordar nuevas realidades los actuales retos tienen que ver con las crisis globales que afrontamos como humanidad y la agenda internacional de cooperación

la agenda dos mil treinta se ha configurado como una agenda universal que compromete a países y regiones ricas y pobres en una tarea de transformación compartida

la desigualdad y el empobrecimiento continúan siendo una realidad para la mayoría de la población del mundo y esta desigualdad afecta con especial contundencia

la cooperación y solidaridad vasca continúan siendo una herramienta fundamental para ejercer la responsabilidad compartida y sumarse a los esfuerzos internacionales

usted también lo ha mencionado las expresiones de solidaridad son tan diversas como los agentes que las promueven reconocer el trabajo y esfuerzo de los agentes vascos de cooperación

pasando por las universidades y centros de investigación y los centros tecnológicos y las administraciones vascas siendo esto así la cooperación descentralizada como la vasca debe emprender su camino de reforma para estar a la altura del contexto y sumarse al nuevo marco de acción de desarrollo

ni ser únicamente una mera financiadora de las actuaciones de desarrollo de los agentes especializados la futura ley de cooperación pretende profundizar en este empeño consolidando las condiciones necesarias para el despliegue de una política pública de calidad que asuma como propia la agenda internacional

hutsuneak identifikatu eta lehengoratu concretamente con la futura ley queremos alcanzar una serie de cuestiones avanzar en una política de cooperación vasca acorde a los desafíos globales actuales la crisis climática la profundización de la desigualdad la crisis sanitaria las migraciones y desplazamientos masivos

estrategikoan pentsatzera behartzen gaituzte en segundo lugar reforzar el compromiso solidario de euskadi desde nuestras señas de identidad

que está basada en la solidaridad desinteresada y en una sociedad organizada y activa en tercer lugar avanzar en la consolidación de una nueva arquitectura institucional que mejore la coherencia y corresponsabilidad entre agentes vascos

inclusivo en cuarto lugar ampliar la base de movilización de los recursos solidarios de euskadi promoviendo una ciudadanía activa un sector diverso y dinámico

con trayectoria y experiencia reconocida nuevos agentes social e institucionales involucrados y unas administraciones comprometidas y activas y por último avanzar hacia un modelo caracterizado por la coherencia de políticas para el desarrollo sostenible que permita el despliegue de la nueva ley desde y al interior de las propias administraciones vascas helburu horiek lortzeko

borondatea islatzen du con este objetivo

durante esta fase contamos con algunos elementos importantes primero con los estudios y diagnósticos sólidos y diversos que se han realizado en los últimos años

pero a la vez señalan retos y desafíos de la política sus enfoques y sus prácticas mención especial merece el informe sobre la ley dos mil siete elaborado por koldo unceta catedrático jubilado de economía aplicada de la universidad del país vasco y fundador del instituto hegoa

ya recogía la necesidad de iniciar una reflexión sosegada

de un nuevo marco normativo estos estudios nos invitan a ampliar el alcance de la cooperación vasca y la consolidación de la política pública que aporte a una agenda de desarrollo

respuestas simples ni uniformes a los retos de desarrollo la agenda internacional nos convoca a fomentar respuestas cooperativas hasta la internacional

con las instituciones vascas y se está trabajando ya en los tres niveles de las administraciones vascas para que tanto las instituciones locales como las diputaciones y el gobierno vasco colaboren activamente en la elaboración de esta nueva ley contamos con el sector de la cooperación se están promoviendo distintos espacios de trabajo reuniones contraste con las ongd especializadas con la coordinadora de ongd de euskadi

y otras comunidades autónomas que también han iniciado sus propios procesos de reflexión sobre sus leyes autonómicas entre otros

y en los países y territorios con los que colaboramos durante los meses de mayo y junio

una de ellas dirigida en concreto a la población juvenil que buscan conocer las preocupaciones de la ciudadanía respecto a la política de cooperación y sus propuestas para la nueva ley y por último estamos también implicando a personas expertas a distintas

en el ámbito de la cooperación de la acción social del género del derecho administrativo tienen algo que aportar y finalmente contamos con el papel clave del consejo vasco de cooperación para el desarrollo las principales conclusiones fruto de los diálogos y propuestas anteriores

y es necesario reconocer el gran valor que tienen los esfuerzos hasta ahora realizados y fruto de ello lo que hemos ido avanzando sin embargo el reconocer nuestra trayectoria

mirar más allá potenciando una política de cooperación con mayúsculas más comprometida que busque la movilización de recursos y agentes suficientes de mayor calidad que parta de diagnósticos y conocimientos profundos de las realidades del sur con las que colaboramos

y aprender la nueva ley vasca de cooperación señor martínez pretende abordar todos estos desafíos y ayudar a la consolidación de una nueva política vasca de cooperación

sailburu no no desfallecemos el cambio evidentemente el cambio de paradigma el cambio de desarrollo es bastante

de cooperación nuestras bueno en las líneas generales podemos tener y

de la reforma y de los cambios podemos tener coincidencias pero bueno el reto fundamental es llevarlo a la letra pequeña nos preocupa especialmente

el gran reto que es hacer los deberes en casa que es el tema de la como le decía al principio el tema de la coherencia de políticas

ni con voluntad política sería un tema fácil pero hace falta un gran consenso y un gran impulso político para poder desarrollar

asuman como propio en el día a día de su acción ese tema

de la participación de agentes sociales y comunitarios diferentes a los tradicionales

de atención a que se repita por ejemplo lo que ha pasado en el ámbito de la regeneración

repsol en este caso a su fundación pero bueno a repsol al fin y al cabo el desarrollo de planes

en euskadi y por tanto ese tipo de agentes sociales que no lo son sino que son empresas privadas no tendrían cabida desde nuestro o no deberían tener cabida desde nuestro punto de vista en la política de cooperación al desarrollo

y lo que a usted le he escuchado y lo que le he escuchado también al director de la agencia no va por ahí pero bueno y a nosotros nos llega también esa preocupación

en este momento y también con el fortalecimiento de la relación y del papel

intervención también de esta pandemia podemos aprender mucho de lo que en otras realidades se hace por ejemplo

cuidados público comunitario que también realidades que se apoyan desde la agencia vasca de cooperación se desarrollan y que podríamos aprender mucho

que hemos intentado y que se van a impulsar en los próximos meses en euskadi sobre el modelo de cuidados y el modelo también por ejemplo de residencias por tanto le reitero que en la letra

podemos estar de acuerdo hay coincidencia también desde las ongd

y con esto acabo fundamental es el compromiso presupuestario de nada nos vale la mejor ley vasca de cooperación la nueva ley vasca de cooperación

si no tiene un compromiso presupuestario que sepamos que se va a cumplir el siete por tanto

dos mil doce y tenemos un debe con esa ley que es una legislación exactamente en el mismo

presentaremos una moción para debatir obviamente

a la vuelta del verano y esperamos que sea también el comienzo de intentar

nos ha trasladado el señor martínez yo creo que las políticas de cooperación son unas políticas importantes y relevantes y el consenso

serían importantes a la hora de poder diseñar y poder aprobarlas no yo considero

sólidas razones para abordar esta nueva ley de cooperación que además tenemos buenos mimbres con el pasado que ya desde el año dos mil siete se instaló y que además la voluntad de este gobierno y de esta consejera es que lo queremos hacer entre todos y todas entre todas las instituciones

de la ciudadanía y sobre todo sí que me gustaría contar también con el acuerdo de los grupos de esta cámara tal y como le he detallado en mi primera intervención la participación está siendo una de nuestras señas de identidad

mucho trabajo que realizar estoy convencida como le decía que tenemos esos mimbres para consensuar una nueva ley

y que dote de amparo legal a una reforzada política vasca de cooperación no renunciamos a lograr un mayor consenso parlamentario que el obtenido por la ley impulsada

ley porque creemos que tenemos una oportunidad para conseguirlo la nueva ley culminará y debe cumplir con dos objetivos claves

con sus mejores recursos y capacidades al objetivo compartido de hacer un mundo más justo más humano y más sostenible y por qué ahora queremos abordar la elaboración de esta ley

positivas y motivos suficientes para poder hacerlo y tenemos que aprovechar la oportunidad primero porque hay un nuevo paradigma internacional para el abordaje de estos desafíos globales en segundo lugar en el entorno de la cooperación porque ya se ha iniciado un proceso en la propia unión europea y en el resto de instituciones

creo que tenemos una trayectoria de más de treinta años de cooperación y solidaridad que nos permite por un lado reforzar esos aspectos centrales de la cooperación vasca pero sí también identificar y restituir algunas deficiencias que también las tiene y tenemos una coyuntura política interinstitucional favorable a la elaboración de esta nueva normativa algunos de los resultados del informe que le mencionaba del catedrático koldo unceta explican de forma muy clara por qué se tiene que hacer este cambio de ley

y cuenta con unos enfoques limitados en cuanto a las coherencias de políticas para el desarrollo también

que en ese compromiso contra la lucha contra la pobreza y la justicia social o la sostenibilidad tenemos que tener una perspectiva que va mucho más allá del trasvase de fondos se requiere de una acción

de los procesos de colaboración y acompañamiento que requieren financiación y creo que la ley del año dos mil siete promueve un modelo de demanda basado

y que limita la participación activa de las administraciones y otros agentes no especializados de la sociedad y eso también tenemos que analizarlo la actual ley no recoge el potencial de una cooperación descentralizada creo que la actual ley recoge una discutible y confusa

la actual ley también establece una definición de prioridades sectoriales

y creo que la actual ley da escasa relevancia a lo que puede ser la rendición de cuentas la transparencia la evaluación

que creo que tenemos que aprovecharla que además en esas encuestas que le decía anteriormente nos importan los resultados

las respuestas mayoritarias que dan las personas y lo que dicen es que la mayoría de las personas que han participado en esa encuesta consideran necesario o muy necesario

alcanzar un acuerdo con ustedes señor martínez con otros grupos parlamentarios de la cámara en el ámbito de la cooperación y en otros ámbitos para poder alcanzar futuros acuerdos que son importantes para

señora artolazabal doña beatriz cuándo piensa el gobierno vasco

proceso de modernización de la administración de justicia en euskadi eskerrik asko gordillo jauna artolazabal andrea erantzuteko zurea da hitza

eskerrik asko mahaiburu andrea el proceso de modernización

que nunca acabará porque siempre habrá que estar adaptándose y que por tanto

podamos dar soluciones a las necesidades que la justicia en euskadi tiene en estos seis meses de legislatura estamos trabajando para la definición y la aprobación antes de que termine este año del nuevo plan de modernización que abarcará hasta el año dos mil veintiséis

van a dar cambio ahora a la implementación de un sistema que denominamos avantius que es el expediente electrónico judicial

telemáticas con los colectivos profesionales de justicia denominada portal de profesionales

tomando en cada momento decisiones para seguir en esta singladura que no tiene fin y que debemos hacerlo

del ámbito estatal por eso hemos decidido llegar a un acuerdo con el gobierno de navarra para ir trabajando conjuntamente entre las empresas públicas

trabajamos también estrechamente con operadores jurídicos sus futuros usuarios para avanzar en las adaptaciones e implantaciones de la plataforma avantius

actual y poner en marcha avantius nuestro equipo ya está inmerso en otra serie de cuestiones que tienen que ver con la modernización y le voy a citar algunas de ellas para que vea

la generalización de aplicaciones de cita previa para los diferentes colectivos y servicios

de puestos para adjudicatura fiscalía personal del instituto vasco de medicina legal letrados de administración de justicia para facilitar el trabajo en movilidad

y estudio de viabilidad del traduce del traductor neuronal judicial

inversiones que en este momento no puedo detallarle por la falta de tiempo también van desde el ascensor del juzgado de vitoria hasta las obras en los juzgados de género

el convenio que vamos a firmar con el gobierno de navarra permitirá una mejor interoperabilidad en la implantación de un sistema homologado con el ministerio de justicia conforme a las actuales normas fijadas por el comité técnico estatal para la administración de justicia

hoy finaliza el plazo para presentación por parte de los grupos de propuestas
y espero que a la mayor brevedad se pueda firmar para poder continuar en esa mejora continua que necesita la justicia vasca eskerrik asko

muchas gracias señora artolazabal por su explicación es verdad que los procesos de modernización de las administraciones son siempre procesos continuos permanentes pero en algunas cosas es conveniente no intentar superar porque fue la construcción de la catedral de colonia que sabe usted que tardó setecientos y pico años

con el tema del expediente judicial electrónico efectivamente nos ha comentado usted que finalmente

hombre ahí se podría haber analizado si se podría haber llegado a lo mejor a un acuerdo entre el resto de comunidades autónomas para hacer un sistema integral

en el tema de la modernización la modernización de la justicia no es solamente el expediente judicial que por cierto no estaría mal que llegara cuanto antes sino que son también las instalaciones mire mirando todas las partidas relativas a la ejecución presupuestaria he visto que de los treinta y cinco millónes de euros que hay más o menos para la modernización de la justicia

de treinta y cinco afortunadamente una parte de estos cinco millónes se han destinado a los juzgados de vitoria a arreglar concretamente el ascensor aunque ya le he dicho que se ha vuelto a romper

algo pasa con ese ascensor en todo caso vamos a hablar

hice una visita a los juzgados de bilbao y además hemos propuesto en la comisión que

y la verdad es que me encontré una situación desoladora señora consejera me encontré unos juzgados

por el edificio de la fiscalía ni le pregunto porque eso ya es para nota pero

son edificios sin ventanas o mejor dicho tienen ventanas pero no se pueden abrir bueno se puede abrir una por planta pero solamente para los temas de seguridad y ahí está y con el tema del covid

los funcionarios están hacinados están rodeados de carritos de la compra donde tienen metidos

no se puede cumplir con los aforos máximos permitidos es decir es que hay demasiada gente metida en los juzgados no hay espacios

hubo como usted sabe un brote de covid hace unos meses y la verdad es que la situación fue tremenda los juzgados de bilbao no pasan una inspección de trabajo vamos ni de lejos

no hablo en concreto de los juzgados de violencia de género que hombre tan sensibles son para todos y particularmente para su departamento donde por la estructura que hay

presuntos agresores y víctimas se tienen que cruzar está bien

lo cierto es que la situación se reconduce día a día pero la verdad es que los juzgados necesitan una intervención y lo antes posible es un compromiso de este gobierno señora consejera a principios de legislatura nuestro grupo firmó con los grupos que sustentan al gobierno un compromiso para instar al gobierno a que sigan en este proceso pero la verdad es que el tiempo ha pasado ya

jueces fiscales abogados usuarios de la administración de justicia es señora consejera para cuándo podría decirme para cuándo está el tema de los edificios le pido por favor que su departamento no demore más no demore más tiempo en arreglar esta cuestión porque cuando se tienen competencias consejera hay que ejercerlas y además hay que ejercerlas bien

la ejecución presupuestaria no tenga ninguna duda que se va a realizar al cien por ciento las necesidades están detectadas y es verdad que tenemos un problema de espacio edificio de los juzgados de bilbao que viene desde hace ya muchos años el objetivo del departamento y así lo hemos manifestado es el de elaborar

edificios donde se prestan los servicios judiciales a la ciudadanía

en la adquisición de unas nuevas infraestructuras próximas a los actuales juzgados de bilbao pero

los espacios que tenemos sí que creo que debería también hablar con las entidades y con los